desde nuestra coalición presentamos esta moción a consecuencia de una interpelación que le hicimos

consejera a la señora san josé consejera de trabajo y justicia isiltasuna mesedez

una moción que es resultado de aquella interpelación que nosotros ya dijimos que viene motivada por un asunto

bastante bastante grave la firma de un acuerdo por parte del gobierno vasco con la patronal

territoriales integradas en confebask un acuerdo firmado por el gobierno vasco con las patronales a espaldas de los sindicatos para tratar y acordar asuntos que conciernen también a los sindicatos y dinamitando de esa manera la mesa existente

social que había sido una de las medidas estrellas de este gobierno en cuanto a la cuestión de las relaciones laborales

especialmente grave las respuestas que nos dio la consejera nos hicieron a nuestro grupo plantearnos presentar esta moción porque si bien la situación pensábamos que era grave las respuestas nos parece que son aún

la firma de este acuerdo como ya expliqué también en la interpelación supuso la ruptura del diálogo social que es uno de los elementos de los que este gobierno ha sacado pecho y en concreto el departamento de trabajo y justicia ha intentado sacar pecho y ha dicho que es un asunto muy importante para el gobierno y al que dice dedicarle mucha atención

de este acuerdo que lo que ha pasado es que se ha despreciado a ese diálogo social sabiendo además que tenemos una situación en la que ese propio diálogo social

correctamente pensamos que se ha firmado un acuerdo al servicio de la patronal que viene a poner de manifiesto algo que también nosotros hemos venido diciendo

que este gobierno es un gobierno que en las relaciones patrones trabajadores es un gobierno que se sitúa de parte se sitúa constantemente

y por lo tanto se sitúa en contra de las y los trabajadores constantemente y la firma de este acuerdo pensamos que ha sido la gota que ha colmado el vaso

que ha sido el elemento que ha desbordado la paciencia de los sindicatos que sí habían considerado oportuno

sindicatos que habían decidido estar en esa mesa de diálogo social

que esto podía tener un coste para ellos porque esa mesa nacía coja porque otros dos sindicatos de los cuatro sindicatos mayoritarios del país habían considerado que la mesa no cumplía los requisitos para poder participar

estaban en la mesa de diálogo social y se han encontrado con el ninguneo por parte del gobierno con la firma de este acuerdo

nosotros pensamos que la respuesta que nos dio la consejera es una respuesta

es inaceptable porque ponía una vez más de parte del gobierno ponía la responsabilidad de los desacuerdos en la parte sindical nosotros le pedíamos al gobierno a ver si era capaz de hacer autocrítica le pedíamos

en cuanto a que dos de los principales sindicatos del país no estuvieran en la mesa

a ver qué responsabilidad tenía el gobierno en esto y a ver qué era capaz de hacer el gobierno para solucionar esta situación y le pedíamos autocrítica en cuanto al hecho

hubieran tenido que salir de ella y nos encontramos con cero autocritica por parte del gobierno y al contrario

con que el gobierno pone toda la responsabilidad en la parte sindical y se limitó a decirnos que no se estaba de acuerdo con la decisión de los sindicatos de salir de la mesa y que estos

cuando ya habíamos oído las razones bien argumentadas por las que se veían obligados a abandonar la mesa por supuesto desde el gobierno

el acuerdo que es una de las peticiones que nosotros hacíamos y que es una de las peticiones que también hacen los sindicatos y se nos

la única respuesta que se nos dio es que el gobierno se plantea realizar una normativa para reglamentar la mesa de diálogo social

qué mesa de diálogo social la que han dinamitado en la que ahora mismo no están las y los representantes de los trabajadores se nos suele acusar constantemente y en concreto se me suele acusar a mí en este parlamento de meterme que algunos consideran que son de exclusividad de diálogo entre patrones y sindicatos y se nos habla hoy de presentar una normativa para reglamentar el diálogo social eso

mucho antes si pensaba que era necesario una reglamentación de las mesas de negociación con los sindicatos y con los empresarios se lo tenía que haber planteado a ellos esa no es solución al despropósito que este gobierno ha llevado acabo por esta razón

una moción que tiene tres puntos son tres puntos muy concretos no pretendemos con esta moción volver a impugnar las políticas generales del gobierno porque eso es algo que vamos a seguir haciendo de manera constante con todos aquellos elementos que no estemos de acuerdo pero son tres elementos que nos parecen fundamentales en estos momentos y desde luego fundamentales si este gobierno quiere tener algún tipo de credibilidad en aquello que dice

al diálogo social y a la participación de los agentes sociales en las políticas públicas

que el gobierno se tiene que plantear como objetivo que los sindicatos participen en ese diálogo social pero eso no se puede hacer con las posiciones que mantiene el gobierno y los grupos que los sustentan eso se tiene que hacer pasos firmes y por lo tanto el primero de esos pasos es la retirada de ese acuerdo un acuerdo que jamás debió existir

y se debe criticar desde este parlamento dicho acuerdo pero no solo por las formas también por los contenidos

como decía ha sido la gota que ha colmado el vaso y que demuestra algo que veníamos diciendo la política de este gobierno es una política antisindical nosotros ya dijimos también con motivo de la interpelación

se viene demostrando de manera constante y por eso los sindicatos todos están continuamente en pie de guerra y con conflictos constantes en diferentes ámbitos en la función pública en diferentes sectores de la función pública

es presentar borradores y no negociar en los sectores privados con un gobierno incapaz de que los agentes

un gobierno incapaz de facilitar que los agentes sociales puedan llegar a acuerdos para llenar de contenidos los acuerdos marcos

a llegar una política antisindical en las políticas públicas de empleo ya dijimos

todos los sindicatos se quejaron de que este gobierno no había contado para nada con ellos nosotros pedimos la comparecencia de todos los sindicatos

y lo hicieron pero además aprovecharon la ocasión para quejarse precisamente de que el gobierno no cuenta con los sindicatos a la hora de elaborar las políticas públicas y tampoco con las políticas de empleo donde los planes de empleo

de los sindicatos a pesar de que el gobierno se esfuerza constantemente en intentar convencernos a los demás

de los sindicatos lo cual es mentira y se demuestra constantemente por eso nosotros pensamos que la política del gobierno es una política erradica pero sobre todo es una política contradictoria no puede ser que constantemente desde el departamento de trabajo y justica se nos diga que es una prioridad absoluta

y los acuerdos tripartitos y constantemente nos encontremos con un modus operandi que es bipartito entre el gobierno y la patronal y que lo que hace es que las políticas del gobierno las dicte la patronal normalmente esto

y las políticas del gobierno dictadas por la patronal se dictan

oscuros pero esta vez el gobierno ha cometido el error de firmar un acuerdo con la patronal que todas y todos conocemos y que ha colmado la paciencia de los sindicatos por eso

los grupos que apoyan al gobierno es una enmienda que no aporta nada y que sobre todo y esto nos parece lo grave es una enmienda que vuelve a situar nuevamente

de la falta de diálogo social en la parte sindical es una enmienda que responde nuevamente a las necesidades de la patronal para justificar y no echar a tras un acuerdo que no solo por sus formas sino también por sus contenidos es un acuerdo contra las y los trabajadores un acuerdo que deja

que tienen que ver con la cualificación con la formación y con la empleabilidad de las y los trabajadores estas son cuestiones que no se pueden tratar

la cualificación de las y los trabajadores la formación de las y los trabajadores la contratación de las y los trabajadores no se pueden

eso es lo que ha hecho este gobierno y eso es lo que propone la enmienda del partido nacionalista vasco y del partido socialista por eso lamentamos profundamente lo que está pasando y nos parece especialmente grave la posición del partido socialista porque yo le dije en la interpelación a la señora consejera que yo creía en su buena voluntad y lo cierto es que cada vez voy creyendo menos en esto porque creo que hay

absolutamente evidente nosotros no aceptamos nos parece un insulto que constantemente se esté apelando por parte de la consejera que es gobierno a la importancia del diálogo social a la importancia de que los agentes sociales y sindicales participen en la elaboración de políticas públicas y no solo el gobierno elabora las políticas públicas sin los sindicatos las elabora con la patronal sino que además en el elemento estrella que se había planteado desde el departamento

de diálogo social donde participasen los sindicatos a esa mesa se le da una patada se la ningunea y se la dice las políticas del gobierno

y luego si quieren ustedes vengan a hablar de lo que ya hemos cerrado el acuerdo con la patronal es un acuerdo cerrado no se puede decir a los sindicatos ahora que vengan a opinar sobre un acuerdo que ya se ha cerrado con la patronal qué le va a decir el gobierno a la patronal si los sindicatos

sentarse en esa mesa para tratar un acuerdo ya cerrado

sobre la mesa todos los elementos con los que no están de acuerdo de ese acuerdo firmado con confebask que son muchos elementos por lo que hemos sabido hasta ahora de lo que ya han expresado los sindicatos qué va a decirle el gobierno a la patronal lo que hemos firmado con ustedes ahora hay que revertirlo hay que echarlo para atrás yo no me creo que este gobierno vaya a hacer eso por lo tanto no son las formas

enorme es un despropósito que viene a demostrar que la política del gobierno está constantemente mirando a los intereses de la patronal

que renuncia a que la política económica del país la oriente el propio gobierno y la orientan los empresarios y las

sin contar con los y las trabajadores nosotros esto no lo podemos aceptar y no podemos aceptar que se haga esto a la vez

desde el propio gobierno que el diálogo social es muy importante y que para este gobierno las centrales sindicales tienen que participar en la política pública

ni a los que son más exigentes con cómo tienen que ser esas mesas ni a los que estaban dispuestos y estaban participando en esas mesas se ha cometido

un error de forma como reconoció el lehendakari lo que se ha evidenciado es las políticas generales del gobierno al servicio de la patronal y contra las y los trabajadores y esto solo se revierte
retirando ese acuerdo y empezando de cero hablando con los agentes sociales eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

kaixo egun on guztioi voy a empezar

aunque no tengo la gracia de mi compañero otero pero aunque sea un tema serio creo que es

se compra el jefe un coche nuevo un cochazo y se presenta con él en la empresa y algunos trabajadores se quedan mirando y admirando ese cochazo se baja y frente a uno de los trabajadores que más cara de admiración ponía le pregunta te gusta el coche verdad y dice sí jefe pues mira si trabajas duro

el próximo coche que me voy a comprar será mejor aún esa es la filosofía de la patronal que tenemos en este país beraiek esaten dute enpresa

la patronal vasca se alinea con los planteamientos más conservadores de la patronal española la patronal vasca hace bueno

más ricas del mundo que decía que efectivamente hay guerra de clases pero esa guerra la está haciendo mi clase la clase de los ricos y además la estamos ganando

la guerra de clases en este país con la ayuda imprescindible del gobierno confebask dice que subir los impuestos a los empresarios es malo

puede perjudicar la recuperación del país y qué hace el gobierno bajar los impuestos a los empresarios confebask dice que es bueno abaratar el despido confebask dice que abaratar el despido ayudaría a la economía

y que las ope masivas desincentivan el emprendimiento confebask no quiere servicios públicos fuertes confebask sí quiere presupuestos pactados entre el pnv y el partido popular y dice que es bueno que haya presupuestos

no hay una voluntad de hacer una política de negar el pan y la

del orden del día de hoy vamos a tener un acuerdo importante sobre políticas de empleo tampoco creemos que los sindicatos estén incluso

estén cerrados en absoluto a llegar a acuerdos y se ha visto que cuando se ponen propuestas encima de la mesa se puede llegar a acuerdos pero es imprescindible que este gobierno abandone la actitud de alineamiento completo y diría más de sumisión completa a los dictados de la patronal para que pueda recuperar la confianza imprescindible

el primer punto en esa dirección sería dar definitivamente por finiquitada la actual mesa de diálogo social e iniciar un diálogo que parta desde la autocrítica del gobierno para tratar de convencer a los agentes sociales de que se puede dar un diálogo social en pie de igualdad y que

todos los contenidos que luego se pasarían a una mesa para cumplir un formalismo

aquellos sindicatos que creyeron que la mesa de diálogo social era un truco para escenificar un supuesto diálogo cuando las cosas se estaban acordando en otro sitio

en torno al acuerdo sobre el empleo rectifiquen partan de cero la verdad es que frente a la sociedad y frente a algunos sindicatos no parten de cero sino que parten

que apueste por superar los problemas reales de salarios de precariedad de deterioro del mercado laboral de empleabilidad etcétera etcétera

egun on guztioi debatimos hoy una moción
presentada por elkarrekin podemos después de la interpelación como muy bien ha dicho su proponente que se realizaron a la consejera de trabajo y justicia relativa a la situación de la mesa de diálogo social

de recuperar la mesa de diálogo social como foro donde encauzar los acuerdos entre agentes sociales los socialistas

esta vía ni estando en la oposición ni estando en el gobierno se lo dijo con claridad la consejera san josé en el pasado pleno de control lo intentó en toda su interpelación y yo se lo pienso reiterar hoy desde esta para los socialistas señor hernández la política pública de empleo y reactivación debe ser acompañada e impulsada mediante el diálogo social consolidando para ello un marco permanente de negociación entre los agentes económicos y sociales

de relaciones laborales tal es nuestra determinación señor hernández que en esta materia hemos incorporado al acuerdo de gobierno entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista y tiene su reflejo en el programa de gobierno que se ha de desarrollar durante esta legislatura

que ha realizado y que va a seguir realizando el departamento de trabajo y justicia con la consejera san josé

porque nosotros creemos firmemente que el diálogo social es el mejor instrumento para la concertación de las policías públicas en materia socio laboral entre el gobierno y los agentes sociales

descreído y tampoco es que yo crea que usted tenga que hacer un acto de fe con lo que le contamos desde esta

los socialistas hemos asumido con absoluta lealtad y convencimiento los acuerdos que se han alcanzado en la mesa de diálogo social tanto en la pasada legislatura como en esta le recuerdo los acuerdos del veintidós de julio de dos mil dieciséis el acuerdo interprofesional de enero del dos mil diecisiete

de relaciones públicas creo que preguntaba usted que para qué reglamentar la mesa pues mire reglamentarla ha hecho usted la pregunta en su primer turno yo le voy a decir para qué para cumplir el acuerdo

el gobierno el departamento ya presentó las líneas básicas con las cuales se tiene que proceder a esa reglamentación para consensuarla con quien hay que consensuarla que es con los agentes sociales

en la búsqueda de acuerdos y en la concertación como método de trabajo seguiremos dedicando todos nuestros esfuerzos y aprovechando todas las herramientas que proporciona nuestro autogobierno para ello lo queremos hacer de la mano de los agentes sociales

sindicales porque creemos que en el diseño de las políticas públicas de empleo y en los derechos laborales se debe contar con el concurso de las organizaciones que representan precisamente a trabajadores y trabajadoras porque así además se acordó en la estrategia vasca de empleo

con todos sin excepción a pesar de que los clásicos ausentes y algunos de sus voceros menosprecien la mesa de diálogo social como órgano válido

hayan mostrado la misma voluntad nunca es tarde para demostrar capacidad de diálogo algo que seguramente sería bueno que fueran tomando nota

han dado sobradas muestras de querer aportar a esas políticas públicas y por eso una vez que el lehendakari ha reconocido el error de haber prescindido de ellos

desde el parlamento también queremos hacer un llamamiento a todas las partes para recuperar la mesa de diálogo social como la mejor oportunidad de concertación

la apuesta por el diálogo social como instrumento válido para defender los intereses de los trabajadores tal y como ellos han declarado muy recientemente

que hay que dar la batalla para que se vuelva al camino que se tiene que volver y que no es otro que el del ámbito del diálogo social concertado por eso insistimos en la necesidad de recuperar el diálogo en la mesa de diálogo social por ello hoy desde este parlamento lo que queremos es colaborar con el gobierno y con los agentes sociales para superar las razones que han provocado su marcha porque yo comparto plenamente con la consejera que no hay ninguna explicación ninguna que pueda estar por encima de la necesidad de que nuestra sociedad cuente con concertación social y con negociación colectiva

para el avance la protección y cobertura de quienes más lo necesitan que son las y los trabajadores por ello aunque a usted le parezca baladí en nuestra enmienda pedimos tres cosas sencillas pero claras y concisas que se adopten las medidas necesarias

oportuna su participación en los espacios de debate y decisión sobre políticas públicas que el departamento de justicia y trabajo consensue y apruebe

remita tal y como se ha comprometido a esta mesa de diálogo social el contenido del acuerdo marco de colaboración por el empleo y la cualificación en euskadi dos mil dieciocho dos mil veinte para qué se lo dijeron también aquí en el pleno pasado lo que pasa que yo no sé si usted

se lo dijeron para su contraste para su mejora para su enriquecimiento para su desarrollo y para su seguimiento una enmienda señor hernández desde nuestro punto de vista propositiva y positiva con un fin claro y conciso la recuperación del entendimiento

la recuperación de la confianza la confianza no se recupera finiquitando los organismos o finiquitando las relaciones sino haciendo esfuerzos y en eso va a encontrar usted siempre a los socialistas para recuperar

en el que las partes puedan concertar de una manera consensuada entre las mismas las políticas necesarias para la incorporación no se olvide usted de los trabajadores al mercado laboral
y para ello necesitamos del acuerdo y la concertación de las dos partes implicadas eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak

moción consecuencia de la interpelación del señor hernández a la consejera de trabajo y justicia formulada en el último pleno de control todos sabemos que en ese pleno

me gustaría de inicio recordar dos citas de esas dos respuestas

eta hobea sortzea es decir una herramienta esencial para conseguir un objetivo vital para nuestra comunidad también me gustaría repasar algunas ideas básicas sobre la cuestión quién qué dónde cuándo y por supuesto cómo el qué qué son las relaciones laborales

formales e informales entre unos sujetos o actores colectivos y que consisten en obligaciones derechos y poderes contraídos entre ellos entorno al trabajo las relaciones laborales constituyen un ámbito compartido entre la sociología la economía el derecho la política la psicología es decir como nos decía la consejera una realidad compleja a su complejidad intrínseca

más complejidad quién mejor quiénes quiénes son estos actores

en la actuación conjunta de tres actores principales las y los trabajadores y sus representantes las y los empresarios y sus representantes y el gobierno el peso específico de cada uno de los actores y las relaciones entre ellos no es idéntico en todos los modelos ni ha permanecido invariable a lo largo del tiempo y no se prevé

esta evolución se detenga es por esencia dinámico y cambiante

y además en un entorno también cambiante más complejo dónde y cuándo en muchos lugares y momentos hoy aquí sin ser nosotros actores principales señor hernández estamos haciendo relaciones laborales y nadie le dice a usted que no las haga bueno el gobierno sí el gobierno es un actor principal cuando nuestra función de impulso en el día de hoy hacemos esas relaciones cómo

cómo hacemos las relaciones laborales o cómo las podemos hacer o mejor dicho

pues las debemos hacer con una fórmula de cooperación de los tres actores en un sentido amplio la fórmula del diálogo social

ante los desafíos que hoy plantea el mundo globalizado y con el objetivo de conciliar

competitividad de las empresas y el desarrollo económico

diálogo social toma de decisiones colectivas basadas en una amplia inclusión de los tres actores afectados por las mismas porque debe estar fundada en la negociación la cooperación y el consenso es decir responsabilidad de todos

desde esas premisas me gustaría responder a dos cuestiones centradas en el objeto de este debate primera cuestión

usted señor hernández y le cito la supuesto importancia que tiene para el gobierno el diálogo social y sin embargo

el gobierno quienes han acabado de dinamitar ese diálogo social hoy también hoy también lo ha dicho lo dijo en su interpelación lo dice hoy señor hernández es una reiterada afirmación injusta además no es cierta y utilizo el argumento de su propia interpelación

en la cual se pasa toda su intervención hablando de dinamitar cargárselo hoy incluso patada por eso le digo que es una afirmación

y sin embargo termina diciéndonos y le cito de nuevo en la realidad de las empresas lo vemos todos los sindicatos del pelo que sean hablan

aclárese señor hernández el diálogo social está finiquitado dinamitado acabado o se está hablando negociando y llegando en multitud de ocasiones a acuerdos aclárese

con la segunda de sus personalidades el diálogo social

en órganos de concertación y la negociación entre los representantes de los trabajadores y empresas ha existido existe hoy y seguirá existiendo no sobreactúe no sobreactúe porque esa sobre actuación le lleva a contradecirse le podría dar multitud de ejemplos de esa sana existencia con sus tensiones efectivamente con sus tensiones derivadas de su complejidad ejemplos de negociación que se produce de forma ordinaria en ámbitos de negociación colectiva tanto a nivel sectorial como a nivel de empresa ejemplos de instrumentos y organismos en los que se dan la participación sindical

consejo de administración de lanbide consejo general de osalan consejo vasco de formación profesional ejemplos en el ámbito de la administración pública

la negociación sigue en la administración pública abierta en todas las mesas tanto en la administración general como en las mesas de educación o en la mesa de negociación del departamento de seguridad sigue

usted sobreactúa y se contradice en su discurso como hoy

frente a esas sobreactuación de su iniciativa nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad

pero desde nuestra óptica tenemos un firme compromiso en favor del diálogo y la concertación social por eso hacemos esa exhortación a todos es para nosotros muy importante además la herramienta mesa

la normativa que regule las funciones contenidos y la metodología de su trabajo

para su evaluación contraste y enriquecimiento porque es un instrumento abierto

y lo hacemos sin sobreactuación señor hernández lo hacemos con las premisas básicas del propio diálogo social

claro y sencillo la segunda cuestión y enlazado con el tercer punto de nuestra enmienda el señor casanova que hoy ha estado muy monologuista

que hoy también ha vuelto a trasladar el mismo concepto al lehendakari ha dejado el gobierno vasco la orientación de las políticas públicas en manos de confebask señor casanova la pregunta se contesta sola

cumple con las políticas marcadas en su programa y este gobierno decide las políticas públicas de empleo y formación aunque a usted le pese esas políticas tienen un objetivo claro y definido crear más y mejor empleo las empresas vascas en su informe del dos mil dieciocho manifiestan que tendrán la necesidad de contratar a cien mil personas en el horizonte en un horizonte

laborales y profesionales que van a necesitar la obligación de este gobierno la responsabilidad de este gobierno es dar respuesta a esas necesidades de empleo y adecuar

un solo puesto de trabajo sin cubrir esa es esa obligación esa es esa responsabilidad y es la mejor respuesta que se puede ofrecer a las personas demandantes de empleo

y que se van a incorporar al mercado laboral en los próximos años

usted a esta acción responsable del gobierno le llama ponerse al servicio de confebask

ponerse al servicio de personas con proyectos de vida ilusionantes usted a esta acción responsable del gobierno le llama actitud de sumisión

hoy también muchas personas no solo yo le llaman tener futuro en mayúsculas

decía inicialmente que las relaciones laborales son suma de interacciones es decir acciones recíprocas entre diferentes actores

en una interacción con tan concretos actores como es esta como son las relaciones laborales los observadores la ciudadanía

enseguida observan esos observadores quién suma y quién resta ustedes

con esto que nos presentan hoy

sin embargo este gobierno con su acción sigue sumando eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

gracias señora presidenta señorías buenos días señor hernández en nombre de elkarrekin podemos

que rechacemos como parlamento el acuerdo marco de colaboración por el empleo y la cualificación de euskadi y que además le instemos al señor lehendakari y a su gobierno a que anulen acuerdo en la parte que les corresponde firmado con los representantes del sector empresarial de la comunidad autónoma nosotros señor hernández no podemos

esta propuesta suya y voy a tratar de explicarle brevemente por qué motivos no la compartimos no la compartimos

instar a romper un acuerdo que se ha firmado

y la patronal un acuerdo que va dirigido al bienestar y a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de esta comunidad

no de que el acuerdo sea malo porque usted no ha venido aquí a criticar poco a poco

ese acuerdo o los objetivos que persigue sino que simplemente nos ha venido a decir que hay que romper ese acuerdo porque organizaciones sindicales no han sido consultadas no se han contado con ellos por lo tanto digamos que por un problema

o de procedimiento comparto con usted lógicamente la importancia del diálogo social la importancia que la representación de los trabajadores tiene que tener

no comparto con usted que tengan que estar presentes en la elaboración de todos los debates y en todas las decisiones de las políticas públicas porque precisamente creo que uno de los problemas que tenemos aquí es el carácter o el rumbo que están tomando las organizaciones sindicales es decir es curioso que si los partidos políticos representan a los ciudadanos los ciudadanos tengan un espectro muy amplio

para los problemas de los ciudadanos pero cuando nos concretamos en problemas muy concretos de los y las trabajadoras de este país resulta que el espectro

porque igual sus objetivos no son precisamente la defensa de los derechos o de los intereses de los trabajadores sino otros intereses diferentes intereses generalmente políticos

debieran defender por eso no comparto su primera o la primera parte de la proposición no de ley que nos trae hoy a debate no digo yo que sea esa ausencia de diálogo social culpa exclusiva de los sindicatos ni muchísimo menos pero sí le digo que creo que desde hace mucho tiempo la ausencia de diálogo

desde luego van más allá o están por encima de los intereses verdaderos de los trabajadores porque en esta ocasión de esta mesa de diálogo social se han ido todos los sindicatos se han marchado todos pero qué ocurriría usted podría imaginar ese escenario perfectamente

el acuerdo sin la central sindical mayoritaria pues tampoco tendría mucho sentido y desde luego muchos lo criticarían y dirían que los acuerdos que se tomen en el seno de esa mesa sin ese sindicato nacionalista mayoritario no tiene sentido

qué sentido tiene qué credibilidad iban a tener esos acuerdos con dos sindicatos minoritarios y qué ocurriría no quiero ni pensarlo si solamente se hubiera quedado uno pues hubiera sido un desastre

dentro de los comités en los que efectivamente están representadas todas las fuerzas sindicales

una se queda y una firma con los empresarios las demás salen a cuchillo no en defensa de los trabajadores sino en las guerras internas de poder

organizaciones sindicales por eso le digo rechazamos ese primer punto de su iniciativa en segundo lugar lógicamente no podemos rechazar por un error de procedimiento que se haya llegado a ese acuerdo cuando ni siquiera entramos a analizar si es bueno o es malo para la creación de empleo y la formación de los trabajadores para un futuro de los trabajadores vascos y desde luego

pedirle al gobierno la anulación de un acuerdo porque perdería por completo la credibilidad

con los trabajadores lo que yo no sé desde mi humilde conocimiento si es que había alguna posibilidad de llegar a un acuerdo o es que había alguna posibilidad de llegar a alguna

no lo sé abrir alguna puerta siquiera dentro de una mesa en la que los intereses de cada uno de los sindicatos por encima de los trabajadores a los que le representan

entiendo que es una tomadura de pelo para la credibilidad tanto del gobierno como para los intereses de los ciudadanos tampoco compartimos señor casanova su postura y la enmienda que ha presentado pero sí comparto

no sé quién es el patrón ni quiénes son los remeros en concreto yo pienso que ahí sí efectivamente están las organizaciones empresariales están los representantes de los trabajadores

pero yo no sé si el patrón son los patrones como ha dicho usted o es el gobierno o no hay patrón la realidad es que cada uno rema a su aire y ese es nuestro problema y este no es un entrenamiento esta es una regata de verdad esta es una regata de verdad en que la solución para algunos parece ser que es tirarse de la trainera ha habido remeros que se han lanzado ya al agua y eso

en una desigualdad de fuerzas frente a los otros que están compitiendo con nosotros

simplemente a la marcha de la economía de otros países aquí

están encima de la mesa si cada uno sigue remando a su ritmo y otros tirándose al agua directamente para dejar de remar el resultado va a ser nefasto y acabaremos perdiendo la carrera

de todos los ciudadanos quizá

culpa el gobierno en esa ausencia de diálogo aquí hemos oído las críticas unánimes de todas las organizaciones sindicales bien cuando nos hablan del empleo público en la que el gobierno es el mayor empleador de la comunidad autónoma de cuando ellos estos sindicatos solicitan la intervención del gobierno para llegar a acuerdos en las mesas de diálogo dirigidas al empleo

privadas esa falta de actitud por el diálogo debiera llevarnos o debiera llevarles a una cierta reflexión este es un ejemplo claro de que efectivamente las cosas no se están haciendo todo lo bien hacerse y por eso en la enmienda que han presentado los grupos que sustentan al gobierno yo creo que falta autocrítica a ese respecto y además pienso que la solución no es

de la mesa de diálogo social lo que hay que hacer es cambiar la actitud empezar de cero y ponerse a trabajar de inmediato un reglamento de esa mesa no va a servir absolutamente

viendo que se ponen encima de la mesa que para qué sirven las leyes para qué sirven los marcos normativos cuando nos los saltamos porque a nosotros nos da la gana y porque nosotros somos

la solución y enviar ese texto a una mesa que está vacía pues tampoco tiene mucho sentido porque para qué para que lo vea el gobierno

que lo han estudiado que lo han debatido que lo han negociado y que lo han firmado lo que hay que hacer es llamar a los que se han ido de esa mesa y pedirles que se sienten y para eso

diferencia de apreciación con el señor casanova creo que no es que la patronal vasca se alinee con la patronal española

al igual que otras patronales en otras partes del mundo capitalista en el que vivimos se alinean con su clase

ha hecho una definición de lo que son las relaciones laborales un tanto

pero las relaciones laborales dirimen intereses de dos grupos intereses que no solo son diferentes sino que son

y por lo tanto en las políticas públicas y los gobiernos es muy importante que ante intereses contrapuestos

sociales en nuestra sociedad no se posicione de un lado de la balanza yo no tendría ningún problema

del lado de la balanza de la clase trabajadora pero los argumentos generales de este gobierno y de otros gobiernos es que tiene que haber un equilibrio

ha roto ese equilibrio además poniéndose constantemente del lado del que de por sí es más fuerte y al que de por sí las reformas laborales

en una situación de fuerza y no no es una cuestión solo de formas

es una cuestión de formas porque precisamente rompe ese diálogo social donde de una manera democrática pueden dirimir esas diferencias de intereses los agentes sociales pero es una cuestión también de contenido

porque habrá ocasión pero porque primero primero los sindicatos

pero ya han hecho alguna crítica al mismo un acuerdo que se ha firmado sin ellos y al que ahora se les pide que hagan sus valoraciones y sus aportaciones el problema de acuerdo es también de contenido

y de manera más breve lo dije el otro día en la interpelación porque pone al servicio de la patronal cuestiones políticas relativas a la cualificación

relativas a la empleabilidad lo pone solo desde el punto de vista de los intereses y de las necesidades

por lo tanto claro que es un acuerdo claro que es un problema de contenido también por eso yo me pregunto nosotros lo tenemos claro para nosotros es un problema de contenido

a decir que eso ha roto el diálogo social y ya se van a encargar los agentes sociales de decir los problemas de contenido que hay en ese acuerdo

de ese acuerdo con confebask porque hoy escuchamos nuevamente a la señora castelo hacer un discurso en la misma línea que está manteniendo el departamento de trabajo y justicia que es un discurso que si hiciéramos fuera del contexto que lo rodea pues claro es un discurso con el que mi grupo estaría de acuerdo

que es lo que estamos diciendo nosotros constantemente y estoy convencido de que el partido socialista

no tragaría con un acuerdo como este por su contenido y por lo que ha supuesto

a los ausentes yo ya lo dije a mí me parece que es inaceptable cuando nosotros estamos hablando de la mesa de diálogo social existente volver a cargar las culpas o justificarse en que hay otros sindicatos que con sus decisiones legítimas han decidido no participar

si estaban en esa mesa con su buena voluntad

por lo tanto no se justifiquen nuevamente en los ausentes y autocritica del gobierno cero el gobierno no se plantea si tiene algún tipo de responsabilidad en que no hubiera de antemano dos de los principales sindicatos del país ni se autocritica en que se haya expulsado de la mesa a los otros dos principales sindicatos

por lo tanto a nosotros nos parece grave esta situación y echar para atrás ese acuerdo yo no sé al señor ruiz de arbulo le parece que sería

no sé exactamente qué expresión ha utilizado a nosotros nos parece absolutamente necesario porque ese acuerdo supone y sí yo lo voy a decir
ha supuesto una patada a los sindicatos que estaban participando en esa mesa amaitzen joan y no se les puede pedir ahora que vayan a aportar sobre un acuerdo que ya está firmado

porque es un acuerdo firmado con la patronal para las necesidades de la patronal y ahora se les dice vengan aquí y digan alguna cosa y vuelvo a repetir qué pasa si los sindicatos dicen

con cuyos contenidos no estamos en absoluto de acuerdo hay que modificarlo de una manera potente qué va a hacer el gobierno

que lo va a retirar que lo retire ahora

que parta de cero porque los contenidos de ese acuerdo tienen que empezar a trabajarlos el gobierno

de cero de esa fórmula tripartita que ustedes alaban eskerrik asko hernández jauna eh bildu casanova jauna zurea da hitza

dicen que un brillante profesor de economía después de terminar una clase magistral

oiga en el mundo real las cosas no pasan como usted nos ha contado y dice sí pero es que el mundo real es un caso particular y nosotros aquí no estudiamos casos particulares hablamos de ciencia y escuchándoles a ustedes hablar de relaciones entre agentes del diálogo social de qué son las relaciones laborales

que no tiene en cuenta lo que ha pasado en este país en los últimos años es que aquí las posiciones de cada cual las conocemos a la perfección

no en términos metafóricos sino en términos matemáticos quien ha restado dinero a los sueldos quien ha restado dinero a las pensiones y quien ha restado dinero a los presupuestos públicos es la actitud y las políticas de la derecha de este país respaldadas por la patronal y respaldadas por los gobiernos de rajoy y de urkullu y el resultado es el que le decía anteriormente

han perdido poder adquisitivo vía salarios vía pensiones y vía menores servicios públicos y eso es lo que está pasando y es que aquí nos conocemos todos y sabemos quién ha hecho qué

de falsa neutralidad porque el gobierno ha secundado las políticas de la patronal en esa dirección se hacía usted la pregunta de qué son las relaciones laborales

bastante académicas pues si en vez de usted nos hubiera preguntado confebask qué son las relaciones laborales yo hubiera respondido como bécquer

la que ha dictado las políticas que determinan las relaciones laborales unas políticas que le permiten tener la sartén por el mango y poner patas arriba la negociación colectiva eso es lo que está pasando por eso decía que no podemos hablar de abstracciones sino de realidades la realidad es que a día de hoy en vigor

y el veinte por ciento están decaídos y el cincuenta y tres por ciento está en prórroga y eso es porque la patronal tiene la sartén por el mango y puede decidir cuándo se renueva un convenio y si no

los convenios decaen y si no le interesa no lo renueva y además fruto de esa política está aumentando su porcentaje de beneficio mientras están bajando

eso es una realidad y el gobierno en vez de alinearse con la parte más débil y en vez de alinearse con los intereses de la mayoría lo que está haciendo es un día sí y otro también

las mismas políticas y decía el culebrón de la fiscalidad en este país es que ha sido evidente lo que ha pasado

al fraude que se le ha hecho a esta sociedad porque confebask no ha permitido hacer una fiscalidad progresiva es que

el deterioro del poder adquisitivo son datos objetivos el hecho de que las relaciones laborales hayan sido impuestas por una legislación desde madrid escrita al dictado de la ceoe es que eso es algo objetivo y lo que ha pasado

uno no va a firmar un acuerdo sobre empleo de carácter estratégico y por el camino dice

ahí va los sindicatos se me han olvidado un acuerdo sobre empleo y se me han olvidado los sindicatos

firma el pnv con confebask eso es el reflejo de una mentalidad

está el pnv y está confebask si es que urkullu lo verbalizó hace un par de años en la realidad solo estamos los empresarios y el pnv o el gobierno vasco dijo en su momento

están fuera de la red es que no se olvida de los sindicatos alguien cuando va a hacer un acuerdo de empleo si tuviera una mínima conciencia

formal sobre el que se han pedido disculpas el problema de esta cuestión no es

a cero y ya sé que es difícil porque hay unos precedentes y hay una pérdida de confianza que está muy cimentada ya y claro si ustedes no solo no son capaces de convencer a los ausentes

sino que desconvencen a los presentes para que continúen evidentemente la papeleta que tienen que levantar es muy complicada aun así como decía anteriormente nik uste dut gobernu batek

un gobierno lo que tiene que hacer es defender los derechos de todos los ciudadanos y procurar los servicios públicos la redistribución de la riqueza y eso significa que tiene que acordar con todas las partes teniendo muy claro cuál es su objetivo eso es lo primero y que sacamos pecho del diálogo social y lo pensamos seguir sacando pero porque estamos convencidos de ello

pero nunca nos hemos asustado ante las cuestiones complicadas otros prefieren

y así lo dicen yo me iría en el minuto uno bueno pues no hay que retirarse nunca ni en el minuto uno ni en el minuto veintiuno porque el diálogo y en una situación compleja como la que estamos no es fácil y eso usted lo sabe

por la situación de costar llegar a acuerdos igual alguien más que nosotros debería de reflexionar cuando lo dice porque de en qué ha consistido o

y cuál ha sido la causa de la ruptura del equilibrio entre las partes igual

y creemos que su origen está muy claro y ustedes señores del partido popular también lo deberían de tener porque eso se llama modificación del estatuto de los trabajadores y cuando ustedes nos dicen que hace falta un cambio de actitud pues es verdad hace falta un cambio de actitud pero un cambio de actitud en el gobierno de españa

muy tarde para reequilibrar y modificar la situación actual y otorgar nuevamente poderes a los sindicatos para poder representar los derechos de los trabajadores porque esa recuperación económica que usted me dice sabe perfectamente que nos queda la parte

de redistribución por ello cuando alguien nos dice al lado de quién nos situamos nosotros lo tenemos muy claro el acuerdo

el acuerdo firmado por lo menos en su objetivo es precisamente conectar esas necesidades de

las personas que están en el desempleo y yo ya sé por qué ustedes no entran

y no entran al contenido concreto porque le voy a leer un párrafo a ver si usted está de acuerdo o en desacuerdo o cree usted que alguna central sindical estaría en desacuerdo con esto

así como desarrollar medidas dirigidas a promover la reducción de las tasas de temporalidad

medidas para el desarrollo de los planes de igualdad en las empresas vascas y para la incorporación de la mujer en los sectores donde se encuentran infrarrepresentadas bueno pues habrá partes del acuerdo

es la flagelación ni pueden usted pensar que la recuperación de la confianza se hace a través de la entrega de un finiquito

ya no existe posibilidad de confianza nunca más por tanto hay que intentar no llegar

ninguna cuestión sino a intentar esforzarnos para recuperar el diálogo y es probable que cuando se ofrece y una vez que se reconoce un error

se da un camino por el que avanzar y el camino que se ha ofrecido para avanzar es que ese acuerdo

yo no sé si habrá o no habrá coste para los sindicatos que participan yo lo que sé es que ellos son los que tienen que acordar y son los que representan a los trabajadores y por tanto ellos tienen que hacer todos los esfuerzos como los tienen que hacer

va de conseguir beneficios beneficios para aquellos a quienes representamos nosotros en el parlamento y ellos en la negociación colectiva donde son actores principales

cuando se dan incrementos salariales cuando se recuperan aportaciones a planes de pensiones cuando se convocan ofertas públicas de empleo diga lo que diga la patronal del sector privado

sí que hay algunas veces en esta cuestión y cuando no entramos a detalles porque hay detalles que son positivos y otros que posiblemente pudieran ser mejorados modificados impulsados y controlados en su ejecución pero bueno para eso sí que es cierto que lo que hay que querer es como les digo no finiquitar

señor casanova hay momentos hay lugares hay situaciones en los que los chistes no aportan

y algunas metáforas tampoco usted nos ha traído sistemáticamente una

insiste con la metáfora ahora tiene un nuevo adepto que es el señor ruiz de arbulo

a mí no me gusta la metáfora de la trainera y no me gusta por qué

por lo que representa de remar juntos sino porque usted plantea esa metáfora por una guerra por el timón y las relaciones laborales no deben ser eso y no son eso desde mi punto de vista el diálogo social

y no es eso con lo cual yo le diría hombre pues

decían los que suman y los que restan prefiero sumar hacer

porque el que hace puede cometer algún error

que no hacer que no ir y eso es autocrítica señor hernández y eso es autocrítica cuando además algo se reconoce un error se reconoce nos decía

muchos viven ustedes viven en el mundo de la abstracción y somos nosotros los que tocamos calle y tocamos la realidad

yo no creo que viva en el mundo de la abstracción yo vivo creo más o menos en un mundo parecido a usted con otras visiones tal vez pero no creo que viva en el mundo de la abstracción y los que no viven de la abstracción son cien mil personas las que no viven en el mundo de abstracción son cien mil personas

con herramientas como esta esos no viven en el mundo de la abstracción para nada

el equilibrio neutralidad alinearse

en las relaciones laborales se produce esa interacción y se produce una interacción de derechos hay derechos hay obligaciones hay poderes

es evidente hay poderes y cada uno legítimamente plantea sus posiciones

se la he explicado es clarísima es gobernar

marcar las políticas públicas de empleo eso es esa es la posición del gobierno ese es el equilibrio del gobierno y es lo que está haciendo si de lo que hablamos es del timón

no del timón de las relaciones laborales del timón de las políticas públicas no tenga la menor duda que es lo que está haciendo

para terminar me gustaría bueno yo sí también pediría

se ha hablado de formas de contenidos hombre hay formas que también podemos llegar incluso a acuerdos en algunas formas señor hernández expulsar

levantarse e irse eso no es expulsar expulsar es otra cosa

yo me levanto y me voy de un sitio tiene que ver con mi voluntad expulsar es otra cosa

ese tipo de imágenes que constantemente nos trae expulsar política antisindical

podíamos empezar también por ahí ese contador a cero también podíamos empezar a ponerlo desde ahí nos decía la consejera que ella no da por fracasado

hay diálogo social pero puede haber mejor diálogo social y ella no da por fracasado esa materialización del diálogo social que es la mesa yo tampoco consejera apostaba junto al lehendakari usted consejera por ese ejercicio cada vez más amplio

de diálogo social por ese ejercicio de ese diálogo social de calidad yo también apuesto por eso y confiaba usted en superar las dificultades y nos decía superaremos estas dificultades y nos decía

gracias señora presidenta tomadura de pelo señor hernández ese es el término que he utilizado yo para definir su petición de que se anule ese acuerdo

a todos los trabajadores y a todas las empresas ese es mi punto de vista y le explico por qué

a insistir en que hay que anular este acuerdo porque se ha dado una patada a los sindicatos

hay que anular el acuerdo oiga mire ese acuerdo

las personas que no tienen empleo lo encuentren y para que las personas que tienen un empleo puedan mejorar sus condiciones de formación para mejorar en ese empleo luego a ese barco hay que montarse no para restar no hay que hundir el barco directamente porque algunos no han querido o no han podido estar en ese acuerdo es así de sencillo yo creo que volvemos

los intereses de los sindicatos como tal sus intereses propios por encima de los intereses de los trabajadores de la misma manera que decía el señor casanova que si se ningunea a la consejera de trabajo porque no está en el acuerdo pero está la de empleo nosotros dijimos al comienzo de la legislatura que entendíamos y creo que ustedes también los dijeron

repartir las competencias entre los dos lo importante no es

y que el gobierno trabaje en conjunto en una determinada dirección eso es lo que yo creo que es realmente importante no quién lo lidere teniendo en cuenta encima que son de grupos políticos o designadas por grupos políticos diferentes lo importante es que esté el gobierno

todos los agentes sociales ahí sí que tendrán que estar los representantes de los trabajadores nada más eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

que decía séneca que no hay viento favorable para el barco que no sabe dónde va claro que posteriormente el gobierno dejó claro que el barco quedaba en manos de confebask en esa galera que nos comentaba

todos esos ámbitos estratégicos del empleo todo lo referido a los jóvenes a las brechas a todas las desigualdades que se están dando ahora en este momento en el mercado laboral quedan en manos

bastante importante y bastante preocupante bestetik

aurrean gaude la cuestión es que ya hemos repetido muchas veces que no podemos seguir haciendo lo de siempre la evolución del empleo y del mercado laboral nos sitúan ante una nueva realidad que condiciona sobre manera los proyectos de vida y de felicidad de los vascos y de las vascas

la economía se recupera al tiempo que fenómenos como la precariedad

podemos compartía este planteamiento sino que también los grupos que sostienen al gobierno seguramente por otros motivos se sumaban a la necesidad en poner la lupa en una serie de elementos muy concretos sobre los que

perspectivas muy diferentes de por qué cada uno pone las lupas donde las pone

sí que parece que había un acuerdo que hay un acuerdo sobre el hacia dónde debe desarrollarse esta estrategia de empleo y creo que

a mí sí se me ocurría pensar cuando leí la enmienda de los grupos que sostienen al gobierno que de alguna forma venían a reconocer esas ausencias

esos puntos de mejora que podría tener la estrategia y la verdad es que me pareció muy interesante que saliéndose

lo que viene haciendo se planteara esa lupa esa lupa que me parecía muy interesante y que además permitía o yo intuí o pensé intuir que podía permitir que pudiéramos llegar a un acuerdo en este sentido y teniendo en cuenta que además desde la presentación de la estrategia pues se ha producido un hito de gran relevancia y como ya decíamos anteriormente

en esta estrategia como es el acuerdo de confebask y la ruptura de la mesa de diálogo pues estamos muy contentas

nosotras también hemos entendido que quizá lo más práctico y lo más efectivo podría ser que esas necesidades de complementación que nosotras observamos en la estrategia se pudieran desarrollar como se os sugería desde los grupos del gobierno a través de los planes

que además hay un compromiso de que esos planes anuales se presenten anualmente y las evaluaciones se presenten anualmente y nos parecía muy interesante que además pudiéramos tener coincidencia

tenía que pivotar la estrategia y nos parecía también interesante

que en esos elementos sobre los que tenía que pivotar la estrategia habíamos

un consenso muy amplio porque de alguna forma eso también ofrece cierta garantía de que la visión es compartida y que esa estrategia

la iniciativa también que discutíamos hoy busca en el contexto

que se recupere ese liderazgo publico que deben tener las políticas de empleo porque esas políticas

para abordar el buen vivir y la felicidad de los miembros de una sociedad y entendemos que eso no puede quedar en manos de otras personas por lo tanto ba nik eskertzea

desde nuestra coalición la verdad es que cuando vimos la iniciativa original la vimos con buenos ojos porque en ella se señalaban algunas de las cuestiones que diferentes grupos

cuando se presentó en el parlamento el plan de empleo

una iniciativa oportuna porque más allá de que los grupos de la oposición en este caso desde luego nuestro grupo parlamentario hayamos tenido una posición crítica con el plan de empleo y así se lo dijimos a la consejera en la comparecencia

pero también un posicionamiento constructivo porque la critica puede ser perfectamente dura y perfectamente constructiva simultáneamente

que creo que en general no gustaron mucho a la consejera pero que en buena medida estaban recogidas también en la iniciativa que presentaba eh bildu

sobre todo para hacer una enmienda a la totalidad no tanto

sino para incluir los elementos que a nosotros nos faltaban de aquellos que expusimos en aquella ocasión y luego

llegar a los acuerdos posibles e incluir los máximos elementos sobre los que nosotros habíamos hablado cuando se presentó

pragmática es una transacción que lo que busca

lógicamente salga adelante y que se acuerde y por tanto pueda incidir

en el sentido y en la rectificación de cómo se va a tener que aplicar

anuales concretos y bueno nosotros esto nos parece positivo porque

en todo aquello que podamos influir desde luego lo vamos a hacer y no nos vamos

yo voy a señalar los elementos que para mi grupo son importantes tanto de lo que hoy se acuerda

que no están recogidos y que son parte de la posición que nosotros hemos mantenido desde que empezamos a mostrar opinión sobre el plan de empleo como elementos importantes desde luego

en la comparecencia de la señora artolazabal nosotros creemos que la transacción de hoy también va en esa aunque nos preocupa que esto va a generar una contradicción con algo que está pasando en estos momentos que es cómo tiene el gobierno planteado la reforma de lanbide que en este momento suscita un rechazo general de todos los sindicatos volvemos un poco también a lo mismo

y al debate de antes nosotros pensamos que esto que está incluido en esta transacción de hoy

pues necesitará un esfuerzo extra del gobierno en el trabajo que tiene que hacer también con los sindicatos de cara a la reforma de lanbide y que nosotros pensamos que no se está haciendo de manera oportuna la prueba es que hoy mismo están de huelga todos los sindicatos no sé si los ausentes o los presentes o no pero todos los sindicatos presentes en lanbide

con esta cuestión otro elemento que nos parece importante de la

es sobre todo que recoge elementos que son destinados a que el plan de empleo mejore en algunos de los objetivos que se nos dice que tiene y que nosotros solemos decir

que son los que tienen que ver con la calidad del empleo más allá de los epígrafes a los que yo me suelo referir y en concreto

para que nosotros firmemos la transacción que es que hablemos de control y seguimiento porque a nosotros nos parece que una de las principales carencias que encontramos no solo en este plan de empleo sino en general y ni siquiera solo con este gobierno sino en general con las políticas públicas de empleo

tengan como resultado realmente empleos de calidad y que haya calidad en el empleo otro elemento desde luego es el que recoge lo que tiene que ver con los sectores y con los sectores de especial vulnerabilidad y que tiene que ver con los sectores feminizados creemos que esto se ha recogido bien creemos que no estaba

y creemos que en esta iniciativa transaccional se recoge bien y creo que eso se podrá llevar a la práctica de una manera mucho mejor que si no se hubiese aprobado esta transacción

por lo tanto nosotros hemos firmado la transacción la vamos a votar lo hacemos

pero creemos que con esta posición constructiva como yo decía que es perfectamente coherente con esa crítica al plan de empleo creemos que aportamos

las políticas que el gobierno quiere aplicar sí sí no sé se ríe la señora

compatible ser crítico con el plan de empleo haber dicho qué es lo que no nos gusta del plan de empleo y luego venir a esta cámara

a incidir sobre las cuestiones que luego ese plan de empleo va a desarrollar lo contrario sería decir que como el plan de empleo no nos gusta nos cerramos en banda y no vamos a hablar ya más de cuestiones de empleo hasta que se presente otro plan de empleo ustedes se ríen porque quizás prefieren que tengamos esa posición si yo me pongo muy crítico me acusan de sobre actuar

no sé no sé a ustedes les molesta lo que digamos sea lo que sea parece ser en fin

les voy a decir porque he dicho que voy a indicar también las cosas que a nosotros también nos parece que también nos faltan y que podrían haber estado

tendentes al reparto del empleo nos parece que es una de las cuestiones que en los planes de empleo y en el plan de empleo no se recogen y que pensamos a nosotros nos parece que son necesarias y que

entre los objetivos ciertos de las políticas de empleo el reparto del empleo

en la transacción todo lo que tiene que ver con que los objetivos sean también racionalizar las jornadas etcétera que va más allá del cumplimiento de la legalidad cuando nosotros hablamos en nuestra enmienda de las treinta y cinco horas como objetivo en las políticas de empleo es porque nosotros creemos que un gobierno se puede plantear en su plan de empleo

de que en el sector privado las empresas apliquen jornadas de treinta y cinco horas es un objetivo como otro cualquiera pero es un objetivo que nosotros explicamos porque pensamos que ese reparto del trabajo se puede garantizar mediante este tipo de medidas que son además una reivindicación histórica ya no solo de los sindicatos sino de la izquierda en general

aquí un poco a reforzar los planteamientos que nosotros hacemos en lo que nosotros creemos que tienen que ser los objetivos

de empleo que es que los resultados de estas no tengan solo que ver con crear puestos de trabajo que no tengan solo que ver como ya he dicho también en muchas ocasiones con bajar la tasa del paro al diez por ciento o al porcentaje que se proponga el gobierno que en este caso es el diez por ciento sino que tenga que ver sobre todo con la calidad en el empleo y por lo tanto todo lo que nosotros podamos aportar para que esas políticas de empleo puedan hacer lo que en los epígrafes sí están diciendo que quieren hacer que es que los empleos sean de calidad y que la política de empleo incida en que los empleos sean de calidad nosotros lo vamos

y cuando nosotros hemos planteado algunas cuestiones sobre la calidad en el empleo o sobre lo que nosotros pensamos que se tiene que hacer para mejorar la calidad en el empleo desde las políticas públicas de empleo muchas veces se nos ha dicho y se nos dijo también cuando se presentó el plan de empleo se nos remitió a inspección de trabajo y se nos remitió al departamento de trabajo y justicia

no se debe remitir solo al departamento de trabajo y justicia y a inspección de trabajo

del departamento de empleo en estos momentos también porque con la legalidad vigente el empleo puede ser absolutamente precario como estamos viendo

en estos momentos que cumplen estrictamente con la legalidad estrictamente con la legalidad y son

es que las políticas de empleo que impulsan y fomentan el empleo no permitan que los empleos

tengan estas características que siendo legales sean empleos precarios y que no tengan calidad ese es

de nuestro grupo con las políticas de empleo y por eso es verdad

separar en dos departamentos empleo y trabajo se ha dicho antes en el anterior debate nosotros también estamos contentos pensamos que es un acuerdo

que eso no rectifica las posiciones críticas que podamos tener los grupos de la oposición sobre los planes de empleo y nos parece que va a mejorar las políticas de empleo

la posición por la que respaldamos esta transaccional eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

señor hernández se me ha puesto usted nervioso yo solo había sonreído

pero es que ha dicho usted que van a influir y no van a quedarse fuera y digo oye es que a mí es que me parece estupendo a ver si es verdad que esa es la dirección que elkarrekin podemos empieza a tomar ya en esta cámara a querer influir

quedarse fuera debatimos en este segundo

que es relativa al plan estratégico de empleo parte la proponente en su justificación de la evaluación del plan de empleo dos mil catorce dos mil dieciséis

debería combinar por un lado un punto de vista estratégico que le llama cualitativo y por otro lado medidas concretas en el ámbito del empleo pero a eso creemos que es precisamente a lo que responde el plan estratégico de empleo dos mil diecisiete dos mil veinte que fue presentado hace dos meses por el gobierno es un plan que respecto al anterior

a la mejora de la calidad del empleo y a la mejora de lanbide

que era lo que había focalizado el plan anterior en una situación económica diferente

en el que se encuentra el mercado vasco con unas perspectivas más favorables en cuanto a la creación de empleo y que no fueron cuestionadas por ningún grupo

el plan y es el propio plan el que recoge que la incorporación de estos objetivos vinculados a la calidad del empleo

responden a la detección de esos riesgos de temporalidad y parcialidad no deseada y a la necesidad de generar oportunidades reales para aquellas personas que mayores dificultades de inserción tienen para generar realmente oportunidades reales a estas personas por lo que se debe incidir en una serie de incentivos

favorables a la hora de su acceso al mercado

le reconoce por la proponente a este plan estratégico lo dice usted en esa justificación amplia que realiza de su proposición no de ley una ubicación conceptual

pero pasa a reglón seguido a poner en cuestión la fijación de objetivos unas veces porque son concretos otras porque son genéricos o para buscar lo que a su entender son claro oscuros

o a la falta de medidas más adecuadas a su entender para afrontar futuro medidas que usted resume en su parte propositiva en las siguientes utilización del trabajo prospectivo medidas de seguimiento y control de las actuaciones visión de género diferenciación de acciones para colectivos con mayores dificultades de inserción laboral o lanbide como herramienta

sobre ese tema de la relectura del plan estratégico pero ahora desde un punto de vista pues igual más crítico y más revisionista con el planteamiento que usted realizaba en esa proposición hecho ese ejercicio y la verdad es que la conclusión a la que he llegado es que el plan recoge

de una forma más concreta menos concreta pero todas

cuál es el recorrido que he realizado en el primero de los puntos trabajo prospectivo me encuentro con el ámbito operativo nueve punto dos que establece que avanzar en el concepto de anticipación resulta fundamental para poder diseñar y planificar

dice la observación y la prospectiva son para ello elementos básicos por lo que se propone como medida de actuación

que desarrolle metodologías para identificar tendencias oportunidades y necesidades del mercado laboral

por lo tanto el trabajo prospectivo el plan ya lo contempla en segundo lugar nos hablan ustedes de medidas de control ámbito establece lo que se llama gestión pública avanzada con una mejora de sistemas de evaluación de todos los servicios de todos los programas para mejorar eficacia y eficiencia e identificar factores de riesgo o de éxito y poder así rediseñar las políticas los programas o las acciones por lo tanto el plan

tercero visión de género esto fue cuestión de debate en la comisión hay un ámbito transversal hablamos de la transversalidad de las medidas

para incorporar esta perspectiva de género en el conjunto de medidas del plan tanto en el diagnóstico de necesidad en la definición y en la planificación de medidas tanto

se podrá luego como digo yo concretar más o menos pero la dirección que nos quieren marcar esa dirección diferente de momento no la he encontrado

ámbitos tres punto uno a tres punto nueve para el colectivo de empleo juvenil que va desde la transición educativa que pasan por el tema del apoyo al emprendimiento el talento joven la formación no voy a explicar todas porque

un par de veces el plan estratégico y luego tenemos el ámbito cinco que va para otro tipo de colectivos

vulnerabilidad y ahí hablamos de desempleados de larga duración hablamos de mayores de cuarenta y cinco años hablamos de las personas con discapacidad entre otros colectivos que también aparece y se recogen quince medidas para estos

no van todos en las mismas líneas de actuación por lo tanto el plan también lo recoge quinto se habla de lanbide como una herramienta eficaz y nos vamos entonces al ámbito

mejora del actual sistema público de empleo para conseguir un instrumento operativo de la política vasca de empleo que ofrezca servicios más orientados a las necesidades de las personas y de las empresas con un diseño del modelo de atención de intervención y de orientación desde un trabajo en red por tanto en el plan ya se incluye también esto se puede mejorar pues sí

no se encuentre en la base de este plan por tanto es difícil cuando me dice que el barco

bien y es cierto se puede mejorar pues claro siempre hay ámbito de mejora pero ustedes saben perfectamente que con la proposición hoy

el plan estratégico porque no se olviden que esto procede la estrategia vasca de empleo también pactada verdad

sociales es esto lo que le estoy diciendo de que la dirección a la que nos vamos a encaminar es la misma y que las novedades novedades no existen pero podremos ir a concreciones o a determinados indicadores mayores o tal en lo que ha hecho posible que hayamos llegado los diferentes grupos como usted muy bien ha dicho

a un acuerdo mayoritario si no es que sea unánime para qué pues para instar al gobierno usted lo ha dicho a que en los planes anuales que han de desarrollar este plan estratégico

determinadas actuaciones que ya están en la base del plan pero que creemos que pueden tener una virtualidad añadida y que además esas

al gobierno y que tienen ellos recogidos como ejes estratégicos concitan una cuestión que es importante hoy en día en el desarrollo de políticas públicas y más en las de empleo es que concitan el consenso

parlamentaria de esta cámara por tanto

de lanbide como herramienta principal establecer objetivos sobre la calidad del empleo desarrollar líneas de apoyo y incentivo en consonancia con lo que esos estudios prospectivos nos digan

o definir estrategias y objetivos para cada colectivo así como

que es algo como digo yo en la dirección de lo marcado verdad de acuerdo con todos y

en un plan de actuación en el que la estrategia que parte de un origen pactado puede seguir desarrollando por tanto yo también voy a mostrar aquí

de los socialistas por conseguir alcanzar un acuerdo tan amplio en una política tan importante y lo décimos porque ustedes y en la comisión también se dijo

y bienvenidos verdad a que nos dediquemos a esto y no a otras cuitas políticas a querernos empezar a mojar quedarnos fuera por tanto celebrar el acuerdo alcanzado en el que como todo el mundo sabe cuando uno quiere llegar a un acuerdo señor hernández siempre

ikaskuntzaren defizita kantitate eta kalitate aldetik se parte de un diagnóstico exhaustivo de la situación real que contamos en el ámbito laboral y se visibilizan los colectivos que peor lo están pasando

jóvenes parados de larga y muy larga duración para darles una ad hoc y efectiva partiendo de su singularidad o características propias como colectivo y además en apartados diferentes como explicaba la señora castelo ekimenaren

neurri zehatzak ditu egoera honi buelta emateko al diagnóstico le acompaña un trabajo de prospección que nos permite obtener los siguientes datos entre los que distinguimos tres categorías las oportunidades claras como pueden ser las generadas por el relevo generacional elementos de duda como puede ser el ritmo

y algunos elementos de peligro o amenaza entre el cual destacamos

las cuarenta y uno directrices estratégicas están estructuradas en seis ejes activación cualificación y competencias generación de oportunidades igualdad de oportunidades empleo de calidad

establece cinco principios totalmente alineados con la estrategia vasca de empleo equidad eficiencia equilibrio territorial participación y consenso y transparencia

la calidad del empleo que se genera es una constante en la preocupación y ocupación tanto del gobierno como de los grupos de esta cámara y de los agentes relacionados con el empleo

incide en este aspecto que es tenido en cuenta en el plan el gobierno vasco

del empleo primando por ejemplo la continuidad en la empresa

dentro del programa lehen aukera o incentivando la contratación indefinida de jóvenes para contratos relevos son algunos ejemplos concretos ya que se suele acusar de que no hay concreciones euskal enplegu zerbitzuaren kalitatea hobetzeko

los objetivos fundamentales del plan estratégico de empleo dos mil diecisiete dos mil veinte

expuestos por la consejera y que solamente voy a mencionar impulsar el empleo de calidad fomentar la inserción laboral a través de los planes locales y comarcales promover la formación profundizar en la educación para que esté más conectada con las necesidades de la empresa facilitar el emprendimiento

derivada del turismo sostenible la consolidación del comercio local y la modernización del sector primario el desarrollo de la economía social y del sector público

velar y generar las disposiciones y condiciones necesarias para mejorar la calidad del empleo y mejorar la aportación de valor de lanbide como principal instrumento de apolítica

es una cuestión recurrente la necesidad de establecer indicadores para poder realizar las correspondientes evaluaciones de los planes que el gobierno vasco asume y contempla y además nos parece adecuado expuesto lo anterior queda claro que la mayoría sino todos los puntos pedidos por bildu en su iniciativa y también algunos de los que incluía podemos en su enmienda a la totalidad ya están contemplados en el plan estratégico aunque

vagos faltos de concreción creemos y nos parece importante

creemos que las posturas de inicio son cercanas que debemos también ser eficaces nosotros y que el plan estratégico de empleo continúe desarrollando todas las actuaciones en el mismo contempladas a nuestro juicio también se ha explicado incluir aspectos como los propuestos por bildu y por podemos en el plan estratégico conseguirían justo el efecto contrario a lo pretendido

ser en perjuicio de las personas de la ciudadanía como no tenemos ningún problema en especificar e incidir y en mejorar en los aspectos que solicitan tanto bildu como podemos estamos dispuestos a recogerlos en los planes anuales

que desarrollaran el plan estratégico y que el gobierno se ha comprometido además a presentar anualmente así como la valoración y resultados que se vayan desprendiendo de los mismos también de forma anual por lo tanto pues tendremos ocasión

cuál es el camino y dónde si es que así ocurriera podemos incidir para seguir mejorando hori dena dela eta

señorías buenos días de nuevo cuando la señora artolazabal nos presentó el plan

desde el grupo hicimos pequeñas críticas no fuimos excesivamente críticos en su presentación porque entendíamos que era un plan

creo recordar que le dije poco ambicioso simplemente y que era mejorable que

muy amplias demasiado generales que concretaba poquito y que sobre todo los objetivos que se perseguían nos parecían poco ambiciosos porque entendíamos que el gobierno tenía capacidad de bajar esa tasa por debajo del diez por ciento esa tasa del desempleo bastante por debajo del diez por ciento y que creciera considerablemente

a la seguridad social es por eso que cuando la señora kortajarena pues nos comentó que iba a presentar esta iniciativa y después la pudimos

completara de alguna manera ese plan para poder colocar indicadores mensurables que se viera viendo a lo largo de la puesta en práctica de la praxis del mismo si efectivamente estaba funcionando o no estaba funcionando o qué había que corregir es decir era una

exclusivamente de oposición nosotros le decíamos que si continuaba la economía como estaba creciendo en el momento hace unos meses

pues que la simple inercia de sustituir a los trabajadores que pasaban a situación de jubilación por jóvenes que se incorporaban a

ese objetivo de bajar el desempleo por debajo del diez por ciento que si además conseguíamos que los jóvenes

fuera de nuestra comunidad y no que se tuvieran que ir por falta de trabajo pues que entonces ya lo teníamos todo conseguido y le pedíamos más y yo creo que con esta iniciativa eso se consigue si conseguimos centrar esas políticas concretas que tiene que ser

en los jóvenes en las personas que tienen escasa o nula formación en el desempleo femenino

sino de mejorar con mucho la calidad del empleo porque son precisamente esos colectivos los que se ven abocados a los empleos más precarios yo siempre digo que la mejor forma de luchar contra la precariedad laboral es la creación de empleo al final el trabajador podrá elegir

y quienes contratan los empresarios tendrán que mejorar con mucho las condiciones de trabajo precisamente para que sean atractivos sus puestos de trabajo para aquellos que están demandando empleo por eso me parece muy interesante y muy positivo y creo que después del debate anterior

los grupos van a apoyar la misma iniciativa el texto conjunto efectivamente donde todos han dejado parte de sus pretensiones para poder llegar a un acuerdo

en el ámbito sociolaboral como comentábamos al comienzo del pleno de esta mañana

el instrumento es lanbide nos ha dicho que va a reformar lanbide igual para conseguir este objetivo necesita algo más que un poquito de una revisión de chapa y pintura igual necesita desmontar el motor entero

la señora garrido mi compañera en estos asuntos nos encontrará siempre para ayudar y colaborar en lo posible por la mejora de las condiciones muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

tiene aquí y también entiendo perfectamente que desde esa función que a cada una le toca las lecturas que se puedan hacer como hoy de las estrategias que tenemos entre manos puedan ser diferentes

también lo puedo entender yo no he dicho en ningún momento que la estrategia no contemple medidas no lo he dicho de hecho las contempla porque si no no sé qué tipo de estrategia

que tampoco sería la primera vez que no concrete absolutamente simplemente digo que con respecto a ese planteamiento que se hace de superar

que era el de la creación de empleo y de sostenimiento del empleo y de superar esa dimensión y abordar otra nueva dimensión que es la de un empleo de calidad

de cuidar y de proteger las relaciones laborales y de atender digamos a las tendencias que el mercado tiene para los próximos años

se planteaban cosas muy generales usted nos ha leído una serie de puntos de ese plan que también son generalidades y que no se concretan

en un contexto muy concreto y es que además ya se planteó en la propia estrategia esa preocupación por hacia dónde va el barco ya se planteó en esa estrategia que ahí había un montón de elementos

en la estrategia y nos comentaba la señora artolazabal no que tuviera un plan sino que lo estaba hablando con confebask que estaba compartiendo esa preocupación con confebask con lo cual

medidas concretas que haya medidas concretas en el plano de una estrategia no quiere decir que no sean generalidades o que no sean vagas que es lo que nosotras interpretamos de la lectura

también se lo comento a la señora arregi con respecto a lo que ustedes planteaban

cuando una dirección está muy bien definida

todo va rápido y la dirección está muy clara

esas virtualidades añadidas a las que se refería la señora castelo tienen que añadirse cuando esa estrategia está aún verde o no está claramente definida por ejemplo con respecto a la prospección me gustaría saber

esta estrategia para superar las situaciones de precariedad femenina que se plantean en un escenario en el que las oportunidades de empleo se van a crear en escenarios

qué estrategia concreta nos presenta por ejemplo para eso este plan aipatzen zigun adostasunetik sortua dela

edozein kasutan iruditzen zait que esta es una iniciativa de sumar que efectivamente lo que hace es

establecer una serie de direcciones que marca además

dirección que además parece que es consensuada y que marca también prioridades

en un reto como es el de la creación de un empleo de calidad que genere oportunidades para todas las personas que ven aquí que supere esos escenarios de precariedad y de luces y sombras que no decía yo sino que eso lo dice sara de la rica que se están generando en este entorno en un entorno

en el que tenemos una precariedad instalada que trae consigo futuros de precariedad y de falta de oportunidades pues creo sinceramente que es un muy buen acuerdo que se debería poner en valor

cuando se acepta que desde la colaboración

que permitan que este país vaya a donde tiene que ir

como curiosidad que hoy me ha pasado aquí es que se me ha dado la bienvenida a un sitio donde ya estaba a nuestro grupo

la señora castelo con muy buena intención nos ha dado la bienvenida ha dicho a

que antes de esta legislatura no porque no quisiéramos o porque no nos parezcan bien las instituciones no habíamos ocupado ningún

público nunca desde el primer día dijimos que íbamos a ser una oposición porque los votos nos habían colocado en la oposición

constructiva y creo que lo estamos demostrando que eso es lo que estamos haciendo desde el primer día y por eso usted sabe que desde el primer día aquí mi grupo ha llegado en ocasiones a acuerdos con los grupos que sostienen al gobierno

llegamos a acuerdos y ni cuando llegamos

estamos haciendo dejación de posiciones críticas ni cuando no llegamos a acuerdos

sobreactuar o jugar un papel yo no sé cuál es el papel que se nos presupone a los grupos

yo creo que el papel de mi grupo tiene sobre todo que ver con el intento de defender las ideas

a través de los contenidos concretos de las iniciativas que discutimos aquí

como en el punto anterior nos parece que el contenido no es posible acordar con los grupos que sostienen al gobierno por la posición que mantienen pues no llegamos a un acuerdo y cuando nos parece que los contenidos son negociables y que podemos defender nuestras ideas llegando a un acuerdo lo hacemos es una posición del grupo parlamentario de la coalición de elkarrekin podemos

y estoy seguro que será también cómo actuaremos cuando estemos en el gobierno próximamente

de la participación de los sindicatos en la estrategia vasca de empleo

el gobierno ha pecado de falta de negociación y de diálogo con los sindicatos y lo han dicho ellos que no me lo estoy inventado yo lo han dicho ellos

hemos dicho antes ausentes y los presentes porque yo recuerdo que lo ha expresado lab

a comisiones obreras que el modo en que se hizo de cara a ellos fue muy precipitado y que no tuvieron ocasión real de poder participar en la elaboración de ese plan

de una manera efectiva antes de que se presentase bueno eso es una crítica que está ahí que

ya me lo dirá en otra ocasión pero me parece que esto también demuestra una vez más lo que veníamos a decir antes que no nos lo inventamos

posición constructiva que no evita ser críticos con lo que hace el gobierno estamos de acuerdo con la transacción y como decía la vamos

creemos que va a permitir mejor o que debería permitir mejor o al menos a nosotros nos va a permitir mejor fiscalizar lo que va a hacer el gobierno a través de ese plan de cara

que desde los planes de empleo se tienen que hacer sobre la calidad de los empleos que motivan lo fomentan o generan este tipo de políticas que para nosotros

es la parte fundamental por lo tanto esa es la posición de nuestro grupo

yo también voy a ser breve página treinta y ocho señor hernández léase cómo se ha constituido el plan estratégico de empleo y ahí aparece

centrales sindicales sí que no tuvieron tiempo que les hubiera gustado más no hablamos de eso estamos hablando de la participación

pero si no quiere esa mesa otro sitio bueno en fin las cosas tienen una forma y un procedimiento revisen revisen que tirar de hemeroteca cuando no se ha estado da mucho yo lo que le digo es que hay que decidir y hacer y cuando le digo yo bienvenidos yo ya sé que elkarrekin podemos cuando viene

me imagino que con la intención de influir lo que le digo es que ustedes han tenido mucho vértigo muchas veces de salir de ese escaño y de influir en las políticas llegando a acuerdos con otras formaciones políticas que en este momento sustentan al gobierno

y datos tengo pero bueno eso queda para las conversaciones particulares que luego si quiere hacemos vacío pero bienvenidos sean ustedes a ese querer influir en esa política donde los socialistas hemos estado

le recomendaría también la lectura del apartado ocho punto cuatro a la

y yo creo que es verdad mire voy a cerrar porque no merece tampoco la pena hemos llegado a un acuerdo usted nos dice que las medidas

concreta o por lo menos quiere llevarte al centro del pueblo ya te buscará luego cómo se va llegando allí

y lo que hoy se ha quedado claro aquí es que la dirección del plan estratégico es correcta y que lo que estamos pidiendo es llegar a esos objetivos de una manera igual más directa o incidiendo en algunos aspectos que consideramos de forma consensuada entre todos

prioritaria o preferentes pero no cambiamos el rumbo y hablamos igual de que algunas cosas son genéricas pero mucha concreción en las

eso es algo de lo que yo he venido reiterando cuando hablamos también de precariedad de cómo revertimos la precariedad

de las medidas concretas con respecto a algunas cuestiones entonces yo me voy a quedar con lo que usted ha cerrado su intervención y es que hay que poner en valor cuando se llegan a acuerdos y cuando se llegan a acuerdos además en asuntos

prioritaria de los ciudadanos y no cuando nos dedicamos a otras cosas fíjese cuando nos ponemos como digo yo con las manos en la harina

dejar posturas maximalistas y llegar a acuerdos entre todos en otras cuestiones cuando son como digo yo más de otros ámbitos

respecto al tema de la dirección el plan la estrategia tienen muy claras cuál es la dirección y para eso se han hecho estudios se ha llegado a acuerdos se ha hablado con los diferentes agentes aquí el gobierno no saca los planes

habla con muchos agentes con sindicatos con patronal con diferentes partidos políticos

unos planes que conceptualmente hasta usted reconoce que son buenos y que le reconozco que después pueda haber mayores dificultades en plasmarlos o en que se puedan plasmar esos resultados

castelo contempla todos los aspectos que usted incluía en su iniciativa original reconocemos que aras de trabajar en la mejora pues bueno que si se quieren especificar de forma concreta como lo hacemos hoy a través de los planes anuales y que además el gobierno ya había asumido el compromiso previamente de venirlos a presentar y

pues esa dirección y esos indicadores que mencionaba el señor ruiz de arbulo pues podrán ser tenidos en cuenta y si acaso

alguna rectificación o alguna mejora pues se podrán también ir implementando

de estos planes anuales y hombre

que se presentaron respecto al tema del desempleo porque

evidentemente ciento veinticuatro mil novecientos cuatro personas registradas como paradas la cifra más baja desde septiembre de dos mil nueve durante el primer cuatrimestre del dos mil dieciocho el nueve coma cinco por ciento de los contratos han sido indefinidos lo que supone un alza del diecisiete coma cuarenta y tres por ciento frente a bi mila hamazazpi

buenos días señora presidenta señores consejeros señorías hace un año desde el grupo

cámara la necesidad de crear un órgano de coordinación interinstitucional de turismo para la coordinación de las administraciones publicas de euskadi que realicen actividades que tengan relación directa con el turismo

ley trece barra dos mil dieciséis que en su artículo cuatro punto diez llama a esa coordinación imprescindible de las administraciones competentes para conseguir de manera efectiva los objetivos de la política turística el gobierno no consideró esta propuesta argumentando que no era oportuno ampliar la estructura administrativa

representantes agencias de desarrollo comarcal

se redujo de manera importante la propuesta inicial y se limitó al turismo

esa coordinación a pesar de asumir la propuesta el gobierno la realidad

donde estábamos el estudio que se ha hecho

celebrados en la comunidad autónoma en los años dos mil quince dos mil dieciséis hay otro anterior un estudio de los años dos mil trece y dos mil catorce que se presentó este estudio último en diciembre del dos mil diecisiete trata de conocer en profundidad la actividad

entre estas ciudades y por ejemplo los eventos según territorio de celebración podemos ver que álava

durante los años dos mil quince dos mil dieciséis ha contado con seiscientos treinta y nueve eventos

dos mil quinientos ochenta y cinco un cincuenta y tres coma ocho por ciento

un treinta y dos coma nueve por ciento aumentan los congresos en trescientos treinta y tres pero la distribución geográfica es similar a la observada por los eventos celebrados en los años dos mil trece dos mil catorce

podemos ver que en álava esos seiscientos treinta y nueve congresos que son el trece por ciento

un siete coma nueve por ciento del conjunto

de esos dos mil quinientos ochenta y cinco congresos han participado

un cuarenta y cinco por ciento del total y gipuzkoa en esos mil quinientos ochenta y tres congresos que son el treinta y tres por ciento

si hablamos de sedes vinculadas al gobierno vasco bizkaia cuenta con el cuarenta y siete por ciento

un diez por ciento la realidad es que el análisis de estos estudios cada cual lo hace a su medida

se constata que la situación lejos de mejorar a empeorado comparando este informe último dos mil quince dos mil dieciséis con el de dos mil trece dos mil catorce y achacaba a que la concentración de sedes institucionales del gobierno vasco y organismos dependientes

generan esta situación cuando eso podemos comprobar que no ha sido así y como les decía gipuzkoa ha tenido el mayor número de asistentes a congresos durante estos dos años

y tiene un diez por ciento de las sedes vinculadas al gobierno vasco por lo tanto este parámetro no es vinculante a la hora

si vamos a eventos del gobierno vasco organizados o participados aquí sí que hay otros datos álava

se han desarrollado el veinte por ciento gipuzkoa el veintitrés por ciento y bizkaia el cincuenta y siete por ciento

en álava el veintiuno coma dos por ciento y en gipuzkoa el diecinueve por ciento

que se organizan en el país vasco yo creo que hay una proporcionalidad y si vamos a aquellos congresos y eventos

organiza el gobierno vasco o en los que participa la proporcionalidad es totalmente distinta y yo creo que nosotros lo que estamos intentando con la iniciativa que presentamos

asuma alguna responsabilidad en este ámbito y propicie que estos resultados sean más equilibrados

y como les decía los datos ponen en evidencia que sí existe desproporción en los eventos organizados por el gobierno vasco diríamos una

entre territorios y esta distribución es similar a la observada por los eventos organizados por el gobierno vasco en los años dos mil trece y dos mil catorce

la desproporción es muy similar es curioso observar como en el estudio

lo que dificulta el estudio y eso sí que es

y eso sí se ve en los datos es decir que en el dos mil trece en el dos mil catorce se aportaron los datos a la hora de hacer el estudio y en dos mil quince

no se aportaron los datos y especialmente en álava como así se reflejan en el propio estudio también me parece

está claro que se ha generado una situación de desequilibrio especialmente en gipuzkoa y me refiero a los eventos que organiza el gobierno y también en álava y así el siete de febrero de dos mil dieciocho las juntas generales de gipuzkoa instaban a la diputación foral de gipuzkoa

en el marco de relación con los otros territorios históricos y el gobierno vasco las herramientas necesarias para solventar las diferencias existentes tanto en la ubicación de las sedes del gobierno vasco como en el reparto de los congresos y eventos organizados por el gobierno vasco a través

territorio si bien en álava como les decía se cuenta con un cuarenta y tres por ciento de sedes vinculadas al gobierno vasco

de congresos como he mencionado antes en álava los asistentes como les decía en dos mil quince dos mil dieciséis han sido de ciento trece mil novecientos veinticinco congresistas y tiene

un cuarenta y tres por ciento de las sedes por lo tanto creemos que este no un parámetro que determina pero también el ayuntamiento de vitoria aprobar la siguiente moción el pleno del ayuntamiento de vitoria reclama al gobierno vasco un reparto equitativo de la elaboración de los congresos en los que participa en la comunidad autónoma

no solo del de turismo nosotros creemos que lo que se palpa hace falta una coordinación y un trabajo en común desde las administraciones que realizan actividades en torno

aquellos eventos que se organizan desde las instituciones especialmente desde el gobierno porque

las actividades del congresos de exposiciones de eventos de reuniones es una

las ciudades por los pueblos porque es un elemento tractor dinamizador de la economía local activa la hostelería el hospedaje los bares los restaurantes el comercio las empresas de servicios una actividad económica

en todos los ciudadanos que hay algunos estudios que cifran en ochocientos sesenta y ocho

o van acompañados con lo cual el gasto

de lo que hace uno que viene solo eso es lo que dice el estudio aumenta un treinta por ciento aproximadamente por lo tanto

desestacionalizan un poco están en periodos de baja opción turística y por lo tanto lo que hacen es

actividades de nuestros núcleos urbanos y con ese ánimo presentamos la iniciativa porque entendemos que en este año no hemos conseguido generar

que se demanda tanto como hemos podido ver en el ayuntamiento de vitoria o las juntas de gipuzkoa porque yo creo que son los dos

territorios más afectados o que se sienten más afectados y por lo tanto creo que es importante que trabajemos en esto y que esto lo tienen que

de turismo del gobierno vasco por lo menos a la hora de organizar y formalizar esta mesa de carácter permanente hemos llegado a un acuerdo y yo quiero agradecer a los portavoces de los grupos de esta cámara la disposición a llegar a un consenso

bastante diferentes y con enfoques diversos hemos llegado a un texto que yo creo que bueno pues que es interesante que puede aportar mucho también a esa mesa

la iniciativa dice lo siguiente en la enmienda de transacción el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que a la hora de organizar sus eventos

además de los criterios referidos al ahorro económico a cuestiones organizativas y a la accesibilidad y disponibilidad de las diversas infraestructuras

que a tal efecto establezca una coordinación entre los diversos departamentos para realizar una distribución equilibrada en sus actividades y en sus diferentes sedes en segundo punto décimos que el parlamento vasco solicita al gobierno vasco

integrada por las diputaciones forales los ayuntamientos de las tres capitales y un representante de las agencias de desarrollo comarcal por cada territorio histórico para el diagnóstico

y el tercer punto décimos el parlamento vasco sostiene que en un espacio geográfico reducido como el vasco es fundamental

que debe ser sostenible y aportar valor añadido tener en cuenta las sinergias y buscar la complementariedad entre los diferentes territorios racionalizando las inversiones y procurando un equilibrio en las mismas

por el acuerdo que yo creo que es positivo y que supone un avance al acuerdo de hace un año

se ponga cuanto antes a trabajar esta mesa muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu larrion zurea da hitza

también tenemos valles absolutamente horadados por vía de comunicación tenemos zonas de concentraciones industriales importantes

y estas son las condiciones físicas pero también tenemos las condiciones económicas las democráticas las culturales lo que es la esencia de este país porque desde luego hay una única forma en que eh bildu afronta este debate y este es del nation branding es decir desde la marca de país

y cómo queremos contar que somos hay países que cuentan con una marca bien desarrollada y sólida que asocian con su evolución con su historia con su contribución a la misma así como muchos otros factores suelen ser también países generalmente de gran influencia cultural

todavía tenemos mucho que hacer en el posicionamiento de nuestra imagen de país por ejemplo el pasado fin de semana nuestro posicionamiento como país no fue vitoria bilbao donostia fue para algunos bertiz pero sobre todo para el mundo entero estuvo en kanbo

hoy venimos a hablar también de una parte de esa estrategia de posicionamiento

tiene que ser un proceso planeados y sistemático además con estrategias que capitalicen nuestra reputación es conocido a lo largo de la historia diferentes referencias el famoso bilbo de shakespeare o cuando en el mundo industrial la referencia el famoso rubio de bilbao el mineral de hierro era el producto que nos referenciaba

el elemento simbólico que nos ha posicionado a nivel industrial ante muchísimos países para muchos por eso la feria es precisamente eso

sin embargo es ese otro referente mundial también sin duda es el zinemaldia

pero creemos que nos hacen falta bastantes más evidentemente la clave es la búsqueda de sinergias y desde la complementariedad entre los diferentes territorios y zonas entendemos que este nation branding lo que necesita es de visión global que respete los equilibrios

esto nos puede llevar a plantear una guerra entre aeropuertos y acabar teniendo infraestructuras sin utilizar como el aeropuerto de castellón

un diseño como país desde la cooperación y el trabajo conjunto y desde luego es este segundo el que defiende euskal herria bildu lo mismo podíamos hablar de puertos la planificación

sin embargo también una crítica que es que muchas veces parece que en turismo haya primado más la actitud del sálvese quien pueda que el de la cooperación y esta marca de país se pueden plantear además diferentes tipos de turismo tenemos un turismo

con unas características socioeconómicas muy concretas y que busca además unos objetivos muy diferenciados hay otro turismo

o la zona de gorbea hay diferentes formas de plantear el turismo lo que necesitamos es esa visión y esa marca de país

porque es muy diferente también cómo se plantea la experiencia como congresista cuando uno va a otros países lo habitual además suele ser

digo ya como usuario digamos normalmente suele haber una relación directamente proporcional entre la distancia que te separa del lugar y la posibilidad de extender tu estancia en esa misma zona pero claro eso también lo harás la extensión de esas estancias siempre se hace en función de que el país de destino

por eso creemos que también este debería ser uno de los indicadores fundamentales a incorporar en el plan de trabajo es decir el periodo

y por tanto de diferentes cursos congresos todo tipo de actividades que promocionan este tipo de eventos mice exactamente lo mismo los cursos de verano es decir

diferentes puntos de atractivo en lo económico en la investigación en lo tecnológico en la forma en que hemos resuelto el problema también de la sanidad de nuestros mayores las referencias culturales

para que pueda aumentar el propio turismo mice es decir el ser un referente en diferentes aspectos provocará que seamos un área de interés y que contribuyamos a que se puedan fomentar

una la real la planificación como país que vamos a ser que queremos ser y

y una segunda la que tiene que ver con el posicionamiento que evidentemente recaerá bastante más ya en la responsabilidad o los responsables de turismo por tanto

y en lo que tiene que ver con las actividades que desarrolla el gobierno vasco pues por una parte a cada departamento empresa pública u organismo

y por eso que sea un referente y a partir de ahí también que distribuya sus eventos de una forma equilibrada y

que recaigan en el departamento de turismo que será un poco el garante de que esto que estamos aprobando hoy se lleve adelante y esto de que aprobamos hoy se lleve adelante ere azken hitzak ere horretara

eskerrik asko señora presidenta egun on denoi hoy nos toca hablar

las portavoces de los grupos que me han precedido en torno a una propuesta presentada por la señora lópez de ocariz referente a la distribución territorial de congresos y eventos

ligadas al mismo esta iniciativa del partido popular pone de manifiesto el desequilibrio territorial existente en el reparto de congresos y eventos organizados por el gobierno vasco así como en el número de sedes instituciones y organismos dependientes

en la justificación que se nos presentaba se aludía a un informe encargado por el ayuntamiento de donosti en el que claramente los datos ponen de manifiesto que la distribución existente en la actualidad no es justa ni equitativa no me voy a repetir porque los datos

muy bien explicados por la proponente pero indicaban en estos estudios

la situación lejos de mejorar había empeorado para el territorio guipuzcoano

cuatro puntos porcentuales y este desequilibrio que

se podía también achacar la mayor concentración de sedes institucionales del gobierno vasco y organismos dependientes en bizkaia álava y según bueno estos estudios

y gipuzkoa tan solo el diez la descompensación es evidente y para poner solución a este

y recomponer el equilibrio territorial desde elkarrekin podemos proponíamos en nuestra enmienda inicial que se pusieran en marcha los mecanismos necesarios

reuniones y otro tipo de eventos siempre dentro de una estrategia turística sostenible y accesible y también para recabar nuevos datos

que nos proporcionaran una fotografía más exacta y más real de la situación que actualmente tenemos con el turismo mice en nuestra comunidad para ello como hemos dicho otras veces es fundamental orientar las políticas turísticas en euskadi hacía un nuevo modelo de mayor valor económico añadido más diversificado desde el punto de vista territorial

pero también hacía un modelo más sostenible desde la perspectiva de su impacto social y ambiental

el auge que se ha producido en el sector del turismo de negocios o el turismo mice

en los últimos años nos debe hacer reflexionar y nos gustaría desde aquí hacer una pequeña reflexión

cuyo motivo del viaje está vinculado con la realización de actividades laborales profesionales

las turistas están lejos de su lugar de trabajo y residencia mientras están siendo pagadas y trabajando desde nuestro grupo parlamentario nos hacemos una serie

que tiene obligaciones ineludibles y objetivos económicos o si de alguna forma no estaremos en muchas ocasiones

por parte del trabajo la extensión de alguna manera de la explotación laboral a todos los ámbitos y momentos de nuestra vida e incluso siguiendo

desde el punto de vista del análisis de los efectos socio culturales

en la sociedad anfitriona los mismos efectos que en el turismo de ocio en cualquier caso no queda más remedio que reconocer que se trata

pero que bien podríamos denominar de viajes pues tiene más que ver con el desplazamiento que con el ocio o con el placer en este sentido el llamado turismo de negocio se ha convertido

de muchos estados y especialmente de algunas de las ciudades más importantes del mundo debido a que es un generador de riqueza fundamental y que tal y como se ha dicho aquí también ayuda a desestacionalizar el sector

pero también como hemos dicho otras veces en esta cámara hay que plantearse para quién y a qué precio ya hemos apuntado muchas veces en esta cámara que el crecimiento desmedido

muchas veces estos desplazamientos a reuniones y actividades solo los pueden realizar personas de alto poder adquisitivo que gastan en servicios de alta gama en la ciudad a la que acuden

analizar todos los factores para poder hablar de sostenibilidad y de un turismo accesible para todas hay que tener en cuenta que es prácticamente imposible que un evento no tenga un impacto medioambiental negativo pero no podemos olvidar los otros dos pilares fundamentales de la sostenibilidad

sobre todo se consume un gran volumen de electricidad se utiliza demasiado papel y se producen auténticas montañas de deshechos en este sentido creemos que hay que hacer hincapié en impulsar también aspectos de sostenibilidad como la prevención de la corrupción la reducción de las emisiones de carbono

a los actos a las instalaciones o al propio evento la gestión

el incentivo en la utilización de las nuevas tecnologías como forma de minimizar el uso

promover el intercambio cultural responsable y ético y el desarrollo local de las comunidades utilizando

para nosotras como hemos repetido muchísimas veces es una cuestión importante y queremos poner el foco en que dentro de las medidas a desarrollar

es una de las cuestiones que tenemos que abordar y que desde nuestro grupo nos gustaría

en el centro de las reflexiones y de las políticas hecha esta reflexión creemos que para impulsar estrategias turísticas sostenibles y accesibles es necesaria

con los distintos agentes socioeconómicos implicados en este tipo de actividades así como la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles administrativos

como el estudio del impacto que estos eventos tienen en nuestras ciudades y de esta forma orientar la actividad congresual

hacia un modelo de mayor valor económico más diversificado desde el punto de vista territorial accesible y más sostenible desde la perspectiva de su impacto social y ambiental por todo lo que he comentado hemos firmado una enmienda de transacción con el resto de grupos porque

la señora lópez de ocariz desde enfoques y perspectivas diferentes y además en esta cuestión del turismo donde muchas veces no hemos conseguido llegar a un acuerdo nosotras entendemos que es importante la búsqueda de sinergias es importante el consenso y es importante abordar los retos

nos ofrece desde un consenso político por ello hemos firmado la enmienda y tal y como ha comentado la señora larrion

y que nos gustaría que todas aquellas cuestiones que hemos planteado no solo hoy sino en otros espacios al departamento de turismo

sí gracias presidenta buenos días consejeros señorías la iniciativa que hoy nos traía el partido popular y más concretamente la señora lópez de ocariz responde a una preocupación

en la pasada legislatura una inquietud que también tuvimos ocasión de analizar aquí como ya se ha dicho en mayo de dos mil diecisiete en esta misma cámara

la preocupación sobre la distribución territorial de los congresos y eventos y también hay que indicar que hay una nítida diferencia entre lo que

y lo que está aconteciendo las juntas generales de gipuzkoa

a seguir generando e incrementando los esfuerzos institucionales en el marco de las relaciones interinstitucionales con los otros territorios históricos y con el gobierno vasco respecto a las herramientas que eran necesarias para solventar las diferencias que estaban existiendo

como en el reparto de los congresos y eventos organizados por el ejecutivo también en vitoria gasteiz ya se ha dicho por la

se ha tratado la necesidad de hacer un reparto equitativo sobre la celebración de congresos

y estas reclamaciones o estas instancias se realizan en base a dos estudios que realiza la empresa ikei que circulan por euskadi desde el año dos mil quince

en los años dos mil quince y dos mil dieciséis fechas en las que todavía no habíamos comenzado esta nueva legislatura parlamentaria

ya lo han dicho también anteriormente se pone de manifiesto cómo faltan algunos datos importantes

coherentes o al menos generales sobre esta historia sobre este asunto partimos del hecho de que la celebración de congresos y eventos de similares características aportan importantes beneficios para las ciudades en las que se celebran yo no comparto muchas de las reflexiones que ha realizado la señora garcía sobre el turismo

pero también es verdad que en estos momentos está absolutamente compensado por los beneficios

los territorios porque haya un equilibrio en esa distribución de congresos pero bueno sirva un poco como mi punto de vista ante la reflexión que nos ha hecho usted aquí

por eso las ciudades quieren las ciudades y los territorios quieren ampliar e incrementar el turismo mice en sus ámbitos

que es uno de los problemas que se está viviendo en lo que puede ser el turismo en general la actividad relacionada con los congresos y ferias se ha convertido por lo tanto en un motor

de muchas ciudades vascas que tienen vocación turística han comentado ustedes cuáles son las estadísticas y los porcentajes pero bueno un hecho destacable el gobierno vasco participó en el año dos mil quince y dos mil dieciséis en un trece por ciento del total de congresos y eventos

directa por parte en los congresos y eventos en dos mil quince y dos mil dieciséis por el gobierno vasco o sus organismos y empresas dependientes del ocho coma siete por ciento

la cuestión del desequilibrio ese ocho coma siete por ciento de los congresos como digo y eventos que organiza

el gobierno vasco y lo digo porque además del momento importante a mi modo de ver en el que se realizan esos estudios en los años dos mil quince y dos mil dieciséis anterior legislatura también los datos tienen su relevancia importante su relevancia específica a la hora de tratar y considerar

nosotros consideramos que la cuestión de las sedes públicas es mucho más compleja de lo que parece deducirse al menos de la iniciativa original y de las enmiendas que los grupos habían planteado

ese peso era del diez por ciento no hay luego una relación directa en cuanto a la celebración de congresos porque las sedes

con esos llamados eventos por los redactores de los estudios que vienen a ser reuniones internas que realizan los funcionarios en las distintas sedes gubernativas y por lo tanto además de que la repercusión turística

son prácticamente insignificantes además poco o nada tiene que ver esas reuniones internas con la vocación turística que tienen los congresos es decir que estamos hablando

de situaciones o cuestiones dispares y creemos que también hay que tener en cuenta que establecer con carácter general un criterio territorial entre otros para determinar la ubicación de una sede gubernativa va a dar sin duda

una distribución mucho más proporcionada mucho más equitativa lo que va a favorecer también una rotación más sostenible de lo que hablaba la señora garcía y mucho más beneficiosa

siempre a otros focos donde están esas sedes del gobierno de los estudios se saca también en conclusión que las reuniones de pequeños formatos esas de menos de cien participantes

casi un once por ciento en gipuzkoa y casi un diez por ciento en álava unido si está relacionado con el tema de las sedes y la ubicación por territorios de esas sedes del gobierno hay una inercia en realizar reuniones es verdad donde se ubican las sedes del gobierno por eso entendemos que tal y como

lo más oportuno es que a la hora de organizar el gobierno vasco los departamentos que además

se determinen esas sedes esa ubicación territorial además de por los criterios del ahorro económico o por cuestiones organizativas y de accesibilidad y disponibilidad de la infraestructuras o equipamientos

ese llamado equilibrio territorial que yo creo que es lo que genera desasosiego y malestar en los territorios que se pueden considerar discriminados de alguna manera

esos congresos por tanto para mí hay dos cuestiones sustanciales

hoy en el acuerdo primero la coordinación entre los departamentos del gobierno vasco

nosotras ya lo dijimos en la anterior legislatura cuando se debatió la ley de turismo cómo era necesario generar unos órganos que coordinasen a los distintos departamentos por mucho que se esfuerce el departamento de turismo comercio y consumo

el criterio de la territorialidad luego hay otros departamentos además de este que realizan eventos y congresos de mucho peso y eso es lo que hay que hacer coordinar

una mesa un órgano consultivo lo va a hacer el propio gobierno

fundamental para que este tema de verdad se pueda llevar adelante y pueda evitarse con ese criterio de territorialidad

que puedan tener territorios y ciudades vascas en esta cuestión del turismo

ofrecimientos formales a diversos departamentos del gobierno vasco para que se atraigan congresos y eventos por lo tanto el tema no estaba tanto en la cuestión

sino que es verdad que había otros como decía antes la señora larrion

que tienen su impacto porque se trata de cuestiones médicas de cuestiones sociales de cuestiones de integración de cuestiones culturales que tienen de cuestiones industriales en fin

que tienen mucho e importante peso como congresos y que

de gobierno pero sí coordinar y creo que es eso el valor que se le puede dar

es esa coordinación hablábamos también de la cuestión de la comisión de trabajo que es el segundo punto al que hemos llegado

que no ha tenido lugar no ha sido posible la celebración o la creación de esa comisión de coordinación interinstitucional para el desarrollo del turismo mice porque

legal que es el de llamarse comisión de trabajo pero sí que ha habido reuniones el diecisiete de noviembre

la cuestión del desequilibrio territorial se expusieron datos de los años dos mil quince dos mil dieciséis y dos mil diecisiete por parte del a viceconsejera del turismo

para intentar coordinarse y sensibilizar a otras tareas del gobierno como digo en aras a que esos congresos tuviesen un criterio territorial bueno algo se ha hecho además está en ofrecimiento de los diversos territorios a los departamentos

cinco barra dos mil quince de marzo por el que se crea la mesa de turismo ahora ya es posible tiene como dos órganos

esa comisión de trabajo por último permítanme yo creo que

sobre cómo deben de complementarse las infraestructuras las inversiones los territorios los hechos los congresos

aquí estamos hablando por los grupos parlamentarios de unos hechos queremos una visión conjunta el lehendakari patxi lópez en su momento siempre habló de tres territorios un solo país nosotros queremos practicarlo luego llegamos a los territorios y cada grupo político y cada partido

de nadie eso es verdad y es una realidad que tendremos que afrontar
pero bueno yo creo que lo importante es que hayamos llegado a un consenso gracias eskerrik asko corcuera andrea

y yendo al grano refutar un razonamiento que me parece extraordinariamente dudoso ya se ha dicho pero las tres precisiones se refieren

en muchos de los aspectos referentes al territorio de araba eso es una laguna la segunda es que reconoce también el propio estudio que de los cuatro mil ochocientos siete eventos congresos etcétera

en dos años hay ochocientos setenta y uno que los tiene sin determinar y eso significa ni más ni menos que el veinte por ciento

que se han podido celebrar en euskadi es una cifra altísima que bueno no digo que descalifica totalmente el estudio pero que lo matiza negativamente si

y luego hay un tercer aspecto que a mí sí que me ha llamado la atención y es que habla de congresos

pero atribuye al gobierno vasco organizados de una manera directa o con apoyo del gobierno vasco un término que es el de eventos y es un término que

y que no aparecen entonces a mí visto luego los datos a los que se refiere cuando habla del gobierno vasco lo que me extraña es porque en lugar de

que son reuniones internas y claro aquí viene el quid de la cuestión porque una de las claves de todo este asunto

se contabilizan para el gobierno vasco un número de lo que se llaman eventos que son en realidad reuniones internas y que no son ni forman parte del turismo mice o sea una reunión del consejo de administración de e i te be

una reunión del consejo de administración de basquetour eso no turismo mice una reunión del clúster de energía

en fin podemos encontrar muchos ejemplos y sin embargo les atribuye

ese razonamiento que para mí es muy dudoso y se dice dado que los eventos

reuniones internas del gobierno vasco y de sus organismos vienen determinadas por la localización de sus sedes

la localización de las sedes y así ese desequilibrio se resolverá lo cual nos lleva realmente

utilizar en sentido contrario bueno pues unos términos que yo creo que de manera justa ella

porque esto que significa que hay que cambiar pues no sé la ley de basquetour

el edificio que tenemos en bilbao venderlo y comprar otro en otro sitio bueno porque hay que racionalizar todo esto y claro

escasamente serio y hay que tener en cuenta además y para mí esto es muy determinante y yo creo que la señora corcuera lo ha explicado muy bien de qué estamos hablando

congresos reuniones etcétera de lo que podemos llamar mice en dos años

los organizados directamente por el gobierno vasco son cuatrocientos veinte es decir

y resulta que de esos cuatrocientos veinte que si miramos el número de asistentes un cuarenta por ciento son menos de cien asistentes

muy fácilmente deducibles que son reuniones internas de esos cuatrocientos veinte claro pues en álava se han celebrado ochenta y ocho en dos años insisto en gipuzkoa ochenta

y para digamos combatir ese desequilibrio en dos años significa que

en gipuzkoa tendrían que haberse celebrado sesenta reuniones más y en araba cincuenta y dos más

esto es de lo que estamos hablando entonces yo lo que pido es una cierta proporcionalidad en relación a las terapias que se puedan proponer o aplicar a la dimensión de los problemas

acusando evidentemente a nadie y además que todo no es el número de reuniones porque una reunión pues no sé de un organismo del gobierno vasco pues ihobe por ejemplo

y quizá la reunión de otro organismo o de un departamento

entonces no solo es el número de reuniones sino también los asistentes

y es lo que nosotros creo que por unanimidad y por eso yo creo que nos tenemos que felicitar

conjuntamente no voy a leer los puntos porque bueno ya se han leído pero bueno en es este último más me refiero al punto uno antes me he referido al dos y al tres

felicitar a todo el mundo agradecer y especialmente a la proponente a la señora lópez de ocariz su flexibilidad y su disposición para

bultzatzeko erbestera joan direnen artean desde el inicio de la crisis y antes incluso miles de personas expatriadas desde euskadi a todos los sitios del extranjero

porque no tenían futuro expatriadas en busca de una oportunidad laboral de un salario digno expatriadas para mejorar su cualificación profesional calculamos que en diez años

irse al extranjero jóvenes con estudios superiores con alta cualificación en su gran mayoría

a esas personas que nuestra sociedad envejecida

necesita su experiencia necesita su fuerza necesita sus capacidades y necesita sus conocimientos

el desarrollo económico sostenible y moderno que necesita este país las necesitamos para construir el futuro

nuestro grupo parlamentario elkarrekin podemos presentamos esta propuesta somos conscientes de que es una propuesta parcial porque no solamente necesitamos a la gente de alta cualificación que se ha ido necesitamos a todos y todas necesitamos a los y las jóvenes que se han ido a los que no son tan jóvenes a todos y todas os necesitamos cada uno y cada una de ellas tienen necesitan merecen la oportunidad algún día pero esta propuesta se centra en aquellas personas de alta cualificación por qué en esas personas porque hay una necesidad nuestro país tiene una necesidad

y la pregunta es cómo atraemos a estas personas el gobierno desarrolló en dos mil quince un programa para traerlas a través de contratos

a ninguna en dos mil quince a una ha sido un fracaso de programa

sino por los resultados por qué no podemos atraer a gente con contratos de cuenta ajena pues evidentemente porque fuera cobran más fuera cobran más mucho más

que en euskadi y porque tienen mejores condiciones laborales

mejor conciliación y tienen más estabilidad laboral y esto es así esto es así

a tener trabajos con becas sin contrato a tener salarios mínimos a tener precariedad rotación de empleos contratos parciales y toda la recua que nos trae la patronal a través de sus medidas habitualmente nola erakarri beraz pertsona hauek nola itzularazi nola

testila makineria han pasado más de cien años desde la última gran emigración al extranjero y la historia se repite en aquella época en el siglo diecinueve miles de vascos y vascas tuvieron que abandonar nuestro país y cuando volvieron

con nuevas ideas hoy en día miles de vascos y vascas se están teniendo que ir a otros países a países industrializados a países social y económicamente avanzados donde han visto otras formas de vivir otras formas de producir otras formas de hacer y ahora tienen ese conocimiento incorporar

incorporarles a través de nuestras políticas de emprendimiento puede ser una buena idea

debe ser una buena idea porque las políticas de emprendimiento que está desarrollando nuestro gobierno tienen limitaciones nuestro país tiene un déficit de emprendimiento a pesar de todo lo que se ha hecho y de todo el dinero que se ha puesto encima de la mesa nuestras tasas de emprendimiento están por debajo de las de la unión europea por supuesto pero también por debajo de la media estatal y estamos por debajo de francia de alemania y de otros muchos países

obteniendo con nuestras políticas de emprendimiento no son acordes con el esfuerzo que ponemos doscientos cincuenta millónes de euros en el plan dos mil trece dos mil dieciséis

el número de empresas creadas apenas creció un uno por ciento y el de personas autónomas no pasó de un cinco por ciento el esfuerzo público además no se ve compensado no se ve acompañado del mismo esfuerzo privado

por lo tanto el esfuerzo que hacemos en emprendimiento no nos está cundiendo necesitamos nuevas ideas necesitamos

como digo tenemos que hacer algo nuevo tenemos que hacer algo distinto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora algo diferente necesitamos innovar también en la cuestión del emprendimiento

traerles a casa traerles para crear prosperidad y oportunidades

gracias señora presidenta buenos días a todos bien tanto por lo que ha comentado

los temas sobre los que gravita una el emprendimiento y otra los jóvenes y los no tan jóvenes expatriados que se van de euskadi y que luego es muy difícil que vuelvan

emprendimiento pues no podemos evitar señalar que euskadi siempre ha sido una tierra de emprendedores pero que sin embargo en estos momentos no nos encontramos en los puestos de cabeza sino que todo lo contrario estamos en los últimos puestos mientras que la tasa emprendedora en españa se situó

en un seis coma dos por ciento subiendo respecto al año anterior

sin embargo en el país vasco no estamos así es cierto que en el conjunto de españa estamos por debajo de la media europea pero también es cierto que en tasas de emprendimiento estamos por encima de países como alemania como francia y como italia en el tema de emprendimiento los datos que voy a aportar

compara el nivel de emprendimiento de la comunidad autónoma del país vasco con otros entornos y lo he utilizado porque es una a base de datos importante que tiene ya catorce años de vida según estos datos en el año dos mil dieciséis

por ciento aunque es cierto que mejora la percepción acerca del emprendimiento hay una mejora en la comparativa de género y se está llegando a un número de mujeres

normalmente el emprendedor se trata de un profesional con estudios superiores y en este momento se está viendo más oportunidades en las mujeres de emprender porque

temor ante un posible fracaso en general tanto entre hombre y mujeres el perfil de la persona emprendedora es de un profesional con formación universitaria con una edad

ideas muy claras sobre nicho de negocio lo que le compensa las limitaciones del potencial

es verdad que aquí en euskadi normalmente el emprendimiento se observa como una oportunidad y como una motivación importante por tener autonomía respecto al proyecto

internacional alrededor del treinta por ciento aunque es cierto que ha disminuido con relación a ediciones anteriores

el señor becerra se basa fundamentalmente en la capacidad financiera de las personas emprendedoras porque

del capital necesario para el negocio y también es verdad que más allá de la aportación de las instituciones incluso la financiación bancaria

emprender se ha reducido y ahora ronda los

euros siendo parecido a la media española es verdad que

en el año dos mil dieciséis que son los últimos datos que se tiene con relación al año dos mil quince es verdad que la valoración de políticas programas infraestructuras para emprender de nuestra comunidad de euskadi es buena pero

de emprendimiento en la educación primaria y secundaria siendo este el ámbito más débil en el ecosistema emprendedor de nuestra

informe recomendaciones que nosotros consideramos importante como era fortalecer las políticas de apoyo al emprendimiento juvenil políticas de sensibilización y concienciación de valores emprendedores y ello acompañado de opciones de mejoras de capacitación

también continuar apostando por la mejora de las herramientas

diseñar un buen curriculum que fortalezca las competencias de emprendimiento e innovación del alumnado en la educación primaria insistir en la mejora y dignificación de la visión social sobre el hecho de emprender también hacer una evaluación de las ayudas públicas que existen en este momento y del impacto de las nuevas empresas

una coordinación del conjunto de las instituciones porque es cierto que todas las instituciones están realizando acciones en este sentido pero que luego quizás por esa falta de coordinación

de tener el fruto deseado porque lo cierto es que como señala también iñaki

y además como decía el señor becerra y decía yo al principio de mi intervención además del emprendimiento hemos hablado del talento

los jóvenes vascos y un talento que este momento pues

se está yendo fuera de euskadi según el observatorio como se decía en iniciativa de inmigración ikuspegi

según la profesora sara de la rica en diez años euskadi tendrá un déficit de cien mil personas porque no solamente estamos perdiendo población como decía

de natalidad más bajas de europa y a ello pues como se ha dicho aquí se une que parte de la juventud sobre todo la más altamente cualificada se va

falta de oportunidades laborales aquí o por falta de oportunidades laborales suficientemente atractivas y que se corresponda con el talento que han desarrollado

o sea lo malo es que al final aquí no vuelven entonces en un escenario demográfico

generacional laboral pues evidentemente no nos podemos permitir

no tengan un proyecto de futuro con lo cual primero tenemos que intentar que los jóvenes no se vayan dando todas esas oportunidades a las que yo me refería que están contenidas en las recomendaciones que el informe de la hacía también tenemos que intentar que aquellos que se han ido un panorama lo suficientemente atractivo en euskadi para que puedan retornar e incluso fichar a personas con los niveles formativos que necesitamos en este momento

nuevo talento para ello es verdad que se han llevado a cabo apuestas conjuntas de empresas instituciones y centros tecnológicos como ha señalado el señor becerra pues por ejemplo a través del programa landhome

también tenemos iniciativas por ejemplo por parte de la diputación foral de bizkaia

sociales han diseñado planes de retorno para estos jóvenes menores de treinta y cinco años desde el partido popular hemos trabajado con el partido nacionalista vasco y con el partido socialista para que fiscalmente también se apoye a los emprendedores y al talento y se han adoptado medidas

innovadores con talento que decidan instalarse en el país vasco o que vuelvan después de unos años pues puedan disfrutar de una rebaja impositiva

está que además figura en la iniciativa el programa bin cuatro punto cero dirigido a nuevas empresas y a empresas emprendedoras

que pretende reforzar ese programa internacional de aceleración y en el mismo sentido está también el programa be basque talent network de la diputación foral de bizkaia

vemos que programas existen que instrumentos hay pero es verdad que como decía el señor becerra pues no acaban de funcionar y que necesitamos un ámbito

señalaba que es verdad que presupuestariamente estamos bien que presupuestariamente destinamos mucho dinero al emprendimiento y al emprendimiento de los jóvenes estamos por encima

y social que no da el resultado que correspondería con el esfuerzo que los contribuyentes están haciendo con sus aportaciones a esos programas como se ha dicho aquí por ejemplo el programa landhome pues es un programa que

los que se preveía que podían existir cuando se hizo el programa aunque también es cierto que hay que reconocer que probamos como el bin cuatro punto cero en la segunda edición ha duplicado los proyectos de la edición anterior con lo cual también vemos

yo creo que la enmienda a la que hemos llegado es una enmienda positiva porque de lo que se trata como decía el señor becerra es no negar

que aquí se apuesta por el emprendimiento pero es verdad que tenemos carencias y que tenemos que entre todos entre todas las instituciones y entre todos los grupos políticos hacer el máximo esfuerzo para

en proyectos de emprendimiento que el que se ha ido que se ha podido formar en el extranjero vuelva y que incluso aquellos que están en el extranjero que no son de euskadi pero sí quieran venir a euskadi porque es

como para que sus proyectos emprendedores aquí puedan tener cabida y resultado por ello yo creo que la enmienda que hemos firmado elkarrekin podemos partido socialista partido nacionalista vasco y nosotros es una buena enmienda y esperemos que luego
eso se fructifique en acciones y en retención y en venida de talento a euskadi gracias eskerrik asko llanos anderea eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

propone un programa de captación de iniciativas de emprendimiento entre personas que quieran desarrollar ideas adquiridas durante su estancia en otros países y que quieran retornar a euskadi y los socialistas vascos en su momento enmendamos junto con los nacionalistas vascos la iniciativa en aras a poder llegar

a un acuerdo que pusiera en valor el plan interinstitucional de emprendimiento de euskadi dos mil veinte porque entendemos que en este tema no partimos de cero y como nadie ha comentado

al acuerdo con elkarrekin podemos y con el grupo populares vascos y nacionalistas vascos y nosotros pues lo voy a hacer yo

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a reforzar y complementar el programa de captación de iniciativas de emprendimiento dentro del marco del plan interinstitucional de emprendimiento de euskadi dos mil veinte

en particular a que con el fin de aprovechar el potencial y la experiencia de aquellas personas de alta cualificación técnica y profesional y mediante el programa

entre otras el acceso a financiación dirigidas a traer a euskadi aquellas personas emprendedoras interesadas en desarrollar sus ideas y proyectos y fijar su residencia en euskadi y a mí me parece que este es un acuerdo que tiene su importancia y que respetando el punto de vista de la portavoz de bildu sí tiene una perspectiva muy genérica no solamente por el ámbito de las personas a las que

no tampoco a los sectores no solamente al sector del emprendimiento aunque también y fundamentalmente sino que se basa en toda una estrategia que ya hay para el retorno de las personas que han tenido que salir o que salieron en su momento

el programa del plan interinstitucional de emprendimiento dos mil veinte no es solamente y exclusivamente el único asunto o plan que hemos traído a esta cámara es que partimos ya de la estrategia vasca de empleo partimos del plan marco

por el empleo y la reactivación económica tenemos el plan interinstitucional del empleo

dos es que es bien reciente hace escasos meses estábamos discutiendo

y ese plan además se basaba en la valoración del anterior plan interinstitucional de emprendimiento y por lo tanto

sino por el ámbito porque se trata no solamente del parlamento vasco del gobierno vasco

el enganche en esta cuestión por lo tanto en euskadi no partimos de cero sino que partimos como digo de muchos y variados planes para que hacer posible o hacer viable que las personas puedan retornar a euskadi puedan encontrar aquí

encontrar fuera lógicamente no hay un cien por ciento de efectividad porque si no efectivamente los planes como landhome hubiesen tenido

pero es que en esta inquietud y en esta preocupación no solamente está euskadi como tal no se nos ha ocurrido solamente a nosotros es verdad que en el congreso por ejemplo de los diputados en febrero de dos mil siete

una proposición no de ley sobre el impulso de un programa de apoyo a jóvenes españoles emigrados para su debate en la comisión de empleo y seguridad como digo del congreso de los diputados otra comunidades autónomas andalucía tiene el programa retorno del talento y desde el año dos mil quince

actuando y trabajando en esta cuestión se diversifican líneas de ayudas en incentivos a la contratación dirigidos en este caso a empresas y en ayuda asociada al traslado de residencia en castilla la mancha también llevan años trabajando esta cuestión con tres líneas de actuación subvenciones para la contratación indefinida dirigidas

subvenciones para iniciar la actividad emprendedora para los jóvenes también específicamente

con la que sufragar gastos de traslados desde el extranjero el principado

para que retorne el talento para el desarrollo de actividades

están las ciudades vascas cómo no también el ayuntamiento por poner un ejemplo de valladolid con un programa pionero que logro el retorno de personas para poner en marcha proyectos empresariales

con ámbitos en innovación en economía circular y colaborativa en industrias culturales y creativas y en internacionalización es decir que son múltiples las

las estrategias las líneas de actuación y los planes que se ponen en marcha como digo tampoco es una cuestión de hacer planes como pollos sin cabeza

en euskadi si de algo podemos vanagloriarnos o estar satisfechos es que primero evaluamos funcionado los planes y luego sobre esa evaluación en aquellas cosas que no hayan funcionado se rectifican se proponen nuevas ideas y yo creo que ese es el valor que se le puede dar incluso hoy

en transacción con el proponente porque no es solamente que el plan

esté ya hecho y ahí hemos acabado nuestra labor no efectivamente ese plan y así se quedó en la comisión y lo sabe el señor becerra está sometido a revisiones anuales y por lo tanto se puede modificar y de hecho es lo lógico para

óptimo que me parece que es lo sensato y lo coherente por lo tanto

las iniciativas y las propuestas que hacía el señor becerra a la que hoy hemos llegado a ese acuerdo como digo porque es un plan además revisable

del capital humano tenía un objetivo estratégico reforzar la capacitación de capital humano emprendedor especialmente en todas las etapas educativas

plantea además como claves el diagnóstico la necesidad de iniciativas de atracción de personas emprendedoras de entornos internacionales y esa línea de actuación tenía como objetivo

internacional con especial atención a aquellos perfiles necesarios para la transformación social y productiva de la comunidad autónoma del país vasco y sus empresas

su experiencia emprendedora atendiendo a necesidades profesionales y personales y esta línea en concreto este eje en concreto de actuación del plan tenía un nivel

es decir el máximo por lo tanto es un compromiso y una vocación que tiene el gobierno y los grupos que sustentamos al gobierno de atajar y de posibilitar

tal y como se fue porque lo lógico es además que en aquellas facetas en las que se ha invertido como es en educación como son

hemos dejado también como tal un dinero que esa formación se marche y no vuelva nos parece en cierto modo desperdiciar un capital

importante y pagado también por la sociedad a mí también quisiera reseñar en el tiempo que me queda algo que también es importante porque muchas veces podemos tener planes magníficos pero luego que estos no lleguen a difundirse realmente a quien es el objetivo el personal al que va dirigido y a mí sí me gustaría dejar constancia de cómo en marzo

a una inquietud que tenía en este caso el parlamentario el señor y desde el departamento de empleo y políticas sociales se le facilitó una información documentada relativa al protocolo para la difusión del programa del retorno de la juventud vasca es un protocolo de colaboración de colaboración entre el departamento de empleo y políticas sociales del gobierno vasco entre confebask con konfekoop y con las universidades del sistema universitario vasco

el programa de retorno de los jóvenes vascos y vascas a centros de trabajo que radiquen en la comunidad autónoma del país vasco por lo tanto creo que sí hay planes sí hay medidas que están además provienen ya de una evaluación previa y con las correcciones y además somos capaces de difundir yo creo que el acuerdo al que hemos llegado hoy es un buen paso

las personas que se fueron en su día retornen a euskadi retornen con su capital y además no solamente retornen que se queden que eso es lo importante también porque uno puede retornar y al final

para que haya una permanencia en ese retorno y luego una última cuestión la cuestión fiscal y

en gipuzkoa se acaba de aprobar la nueva normativa fiscal en bizkaia y en álava se hará próximamente y en esa nueva normativa fiscal en esa reforma fiscal

dos artículos para el irpf y uno para el impuesto de sociedades en los que específicamente se habla de la posibilidad de facilitar fiscalmente

es importante porque ya es una normativa puesta en marcha ahora hay que ver cuál es
la efectividad que tiene esa medida nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

migratorios de la juventud nacida en euskadi de

ir al extranjero de la juventud de dieciocho a treinta y cuatro años eta konklusioa hau da la mayoría de quienes tienen experiencia laboral en el extranjero se fue para realizar prácticas con becas de estudios o para vivir nuevas experiencias y seguir aprendiendo idiomas solo un siete coma nueve por ciento

talde bat da se fue por falta de trabajo nik uste dut

de alta cualificación hori horrela da

guzti hori bultzatzeko tanto a personas expatriadas como a no

no nos sirven solo iniciativas firmadas con aquellos que ponen dificultades apur bat ideia hori izan da

izan genuen eztabaida las tasas de emprendimiento

al que usted hace referencia señora llanos lo que señala es que el nivel innovador de las empresas vascas de nueva creación

un nivel superior a la media europea y estatal y la innovación está más presente en las empresas de nueva creación que las empresas consolidadas

que garantiza el acceso de start up a clientes industriales del más alto nivel

hori bakarrik esateko pero es cierto que nuestra iniciativa venía del debate del plan de emprendimiento

el debate del plan de emprendimiento sí que creo que tiene sus puntos débiles la señora llanos también los ha mencionado

no los vamos a analizar aquí pero es cierto que una de las aportaciones que hacía nuestro grupo en concreto la número tres iba en este sentido ustedes además estaba la señora corcuera allí delante también la leyeron y dijeron bueno

leerla con detenimiento hay que analizarla les hemos dado cinco meses y hemos entendido que procedía a hacer una proposición no de ley porque había que analizarla pero con una cierta urgencia por qué con una cierta urgencia

años y años y algunos llevan ya diez años están haciendo sus propios proyectos vitales en el extranjero

entonces nos urge como país activar las políticas de retorno de esa gente que se ha ido de ahí que presentásemos una proposición no de ley no tanto para enmendar el plan de emprendimiento como tal sino bueno pues para desarrollar una iniciativa que nos parecía interesante

sí tengo que decir que es cierto que el plan landhome

si tratamos de traer a gente que está cobrando más en el extranjero

y por eso digo que la solución no está en firmar pactos con la patronal porque necesitamos cubrir cien mil puestos de trabajo con esa misma patronal que pone unas condiciones salariales y laborales

pero bueno también ese es otro debate que hemos tenido en el primer punto no procede sí es cierto que dentro de su enmienda

yo ahora sí le voy a dedicar un tiempo ustedes planteaban como solución el plan cuatro punto cero ese programa sí tiene su interés tiene su interés para atraer talento internacional start up tiene su interés pero también tiene sus lagunas

tecnológicas bueno las atraemos relativamente porque no es lo mismo atraer

de unas instalaciones productivas que a traer un start up que hoy está aquí

el capital no tiene arraigo el capital solo tiene interés entonces

porque lo que pretendemos es arraigar proyectos

que son vascos y vascas también es cierto que en nuestra iniciativa inicial planteábamos que fueran del estado porque también es cierto que su arraigo será mucho mayor que

una de las iniciativas apoyadas en dos mil dieciséis era de la india

esta en las finalistas había una de china una de ucrania dos de francia dos de portugal una de canadá vuelvo a repetir es interesante traer esa gente pero garantizar su arraigo es mucho más difícil que si lo hacemos con empresas creadas por vascos y vascas

y bueno de ahí venía y coincido perfectamente con lo que ha dicho la señora llanos atraer start up que atraer talento el talento viene de la mano de ideas

ha podido conocer otros mundos otras realidades otras sociedades otras formas de trabajar de vivir de producir

es que tenemos dinero tenemos una infraestructura incluso sobre dimensionada desde mi punto de vista

y de ahí el interés también nada más muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

señora presidenta con su permiso desde el escaño simplemente al señor becerra decirle efectivamente de lo que se trata es de combinar todo no solamente traer

start up sino de traer también talento traerlo evidentemente como decía si son vascos que se han ido al extranjero traerlos tiene mucho más arraigo es más fácil

es cierto yo creo que su iniciativa en ese sentido y por eso creo que la

que hay que analizar cuáles son las cuestiones que tienen ámbito de mejora y mejorarlas y ver que igual

nuevas a la señora etxebarrieta es verdad que

estamos de acuerdo aquí se hablaba de dos cuestiones de emprendimiento como fórmula de dar oportunidades a los jóvenes y del talento y del retorno del talento pero también es evidente que habrá que buscar fórmulas

del emprendimiento y de que se trata de que también no solamente el talento sino también todos aquellos que se han ido a buscar proyectos de futuro fuera de euskadi

específico y parcial que no impide que también se puedan tratar pues cuestiones más generales y a la señora gorospe solo decirle que nosotros reconocemos que aquí hay cultura y hay de emprendedores

por parte del gobierno apuesta económica y apuesta institucional

de lo que se trata es de entre todos como decía en mi primera intervención buscar fórmulas para que todo ese esfuerzo económico institucional que se está poniendo sobre la mesa tenga más frutos que los que está teniendo en este momento nada más muchas gracias

tan solo para aclarar algunas o hacer algunas precisiones yo no he comentado

no fuera interesante al contrario comparto y le felicito de que lo hayan podido presentar para que hubiesemos podido llegar a un acuerdo

porque también compartimos la necesidad del arraigo de los proyectos

que nuestra enmienda se había quedado corta evidentemente para luego iniciar el proceso de debate y negociación con los grupos y poder hacer algo

hemos dado lugar al acuerdo en esa enmienda a mí sí me gustaría dejar claro por otra parte que esto no es algo improvisado a lo que hayamos podido llegar a un acuerdo pues porque a la señora gorospe y a mí nos ha venido así en gana hoy sino que parte del hecho de que hay un acuerdo de gobierno

en el que señalamos que para esta legislatura hemos dejado muy claro que

y un nuevo modelo de relaciones laborales más transparentes son elementos claves para la competitividad de nuestra economía y lo digo porque me parece que a veces nos olvidamos cuando

para luego poder hacer ese plan de emprendimiento interinstitucional dos mil veinte para hacer ese plan por el empleo y la reactivación económica por hablar de la estrategia de empleo y por toda una serie de planes que tienen además en unos apartados específicos hablan y tratan de acciones y de líneas estratégicas para fomentar e impulsar el retorno

y poder participar del desarrollo de la sociedad vasca por lo tanto creo que es fundamental el que seamos capaces de poner líneas de llegar a acuerdos

amplios los consensos que podamos tener en esta cámara respecto a este tema porque en ello nos va mucho

es el lastre y el miedo al fracaso este país tiene cultura de talento pero tiene miedo al fracaso y estigmatiza a las iniciativas que fracasan y eso en el ámbito de emprendimiento es un problema que tenemos que superar un cambio de valores

que arriesgar es bueno y que el que cae se levanta y tiene más oportunidades para seguir avanzando

señor becerra a las start ups de ediciones anteriores que habían sido elegidas

destacando que muchas de ellas pues no eran de aquí que eran de lugares que estaban lejos todos son

y usted decía que cree que dificulta el arraigo pero a nosotras y a nosotros a nuestro grupo parlamentario estoy segura que a quienes sustentan el gobierno también y a usted

no le cabe la menor duda de que quien conozca euskadi

esta tierra su cultura sus oportunidades su calidad de vida sus gentes elegirá se enamorará de euskadi y tiene muchas probabilidades